gracias señora presidenta señor lehendakari señores miembros del gobierno señorías la política vasca como la de muchos otros lugares en el mundo

pero como le decía efectivamente estamos ante el desafía de movimientos radicales y populistas que están en esta misma cámara

y le expliqué que la línea divisoria hoy ya no está tanto entre nacionalistas y no nacionalistas que por otro lado están compartiendo gobierno sino

y los populistas y radicales y que desde nuestro punto de vista eso obliga a su gobierno a realizar una elección clara respecto del lugar que quiere ocupar

buscar hay grupos en esta cámara que aspiran a liquidar el régimen de derechos y libertades y los marcos de convivencia que nos hemos dado desde la transición

y portadores únicos de una voluntad popular que consideran por encima de la ley del derecho y de las mínimas garantías democráticas le diré

pensamos que juntos por encima de legítimas diferencias podemos contribuir a hacer de euskadi una sociedad cada día más abierta y prospera

e iguales en derechos y deberes donde pueden convivir gentes de distinto origen lengua o condición o sentimiento de identidad es más

cuando se garantiza la pluralidad la diversidad y la diferencia y se establecen sistemas que protejan a los ciudadanos del abuso de poder y de la arbitrariedad para nosotros la diferencia no lleva a la separación sino a una convivencia basada en el respeto que busca objetivos compartidos y que utiliza el diálogo

y por eso su primera obligación como lehendakari es defender la pluralidad y combatir el populismo naturalmente

una facción radicalizada pretende la secesión de aquella comunidad saltándose la ley y todas las garantías democráticas invocan una mayoría social inexistente en nombre de cuya voluntad quieren imponer un proyecto que excluye de la convivencia a todos los que no piensan

que no de votos y la han utilizado para atropellar los derechos de los diputados del parlament incumplir sus propias leyes y reglamentos prescindir de cualquier forma democrática aprobar leyes que derogan la constitución y su estatuto de autonomía y convocar un referéndum

y el derecho del conjunto de los españoles a decidir qué quieren que sea su país

y en la incertidumbre entenderá que este tema que en el resto de españa preocupa a todos aquellos

ni que una parte pueda decidir por el todo en el país vasco nos provoca aún más desaliento sabemos en euskadi de las consecuencias de proyectos rupturistas que han dividido y enfrentado a la sociedad sabemos que las aventuras soberanistas

sino más esclavos de una realidad identitaria que todo lo invade y todo lo contamina

que la aparta de la democracia que vulnera nuestra legalidad y que quiebra nuestro modelo de convivencia

pero por fin reconoció que el referéndum ilegal de cataluña no cumplía las garantías debidas después de este gesto de respeto a las reglas del juego democrático

en que en esa lógica respaldaría al gobierno de españa en todas sus iniciativas para garantizar la democracia el problema es que sus compañeros de partido ya para entonces habían viajado a barcelona y se habían envuelto en la estelada incluso después de esa declaración de principios una delegación del máximo nivel

legitimando un proceso que se aparta de nuestro orden constitucional fíjese

y garantizar la democracia y las libertades y ustedes

han reaccionado cerrando filas con lo más radicales en contra de la actuación de jueces y fiscales en las últimas semanas miembros de su partido dedican más tiempo a compartir pancarta con bildu podemos esquerra republicana y la cup que a cualquiera otra actividad por cierto

que son objeto de amenazas intolerables por cumplir la ley a dónde se puede llegar lehendakari con semejantes compañeros de viaje no se habían presentado ustedes y confío en que esa sigue siendo su voluntad como garantía de moderación frente a la expulsión de los radicales invoca usted hoy

la necesidad del diálogo y de la negociación y quiero decirle que diálogo es lo que se vino ofreciendo paciente y reiteradamente hasta que por la vía de los hechos

se lanzaron a la ruptura definitiva esa ha sido su respuesta su única oferta de diálogo es que se acepte su disparate

y que los poderes del estado se humillen ante sus imposiciones

que la democracia no puede ser objeto de transacción ni tampoco la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes

y se expone a una pena eso sí con todas las garantías judiciales

vuelvan a la sensatez democrática desconvoquen el referéndum y entonces sí

dentro de los cauces de la ley mientras tanto lo importante es garantizar los derechos de los ciudadanos de cataluña y del conjunto de los españoles

que en el momento decisivo cuando hay que elegir elijan ustedes ponerse del lado de los más intransigentes

porque esa actitud constituiría un riesgo para consolidar lo que hemos venido construyendo en los últimos tiempos a través de un diálogo fructífero y porque esa es

a la convivencia también en el país vasco usted sabe mejor que nadie de la voluntad de diálogo del gobierno de españa y la del partido popular es más

es usted la prueba viviente de ese diálogo y no parece que le vaya mal de esa manera pero hoy nos ha dejado preocupados ha definido lo que ocurre en cataluña como un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias

del conflicto a la que son tan adictos los nacionalistas como si quisiéramos olvidar que los conflictos

y que en realidad la democracia es una manera de encauzarlos desde la razón y el derecho ese mundo utópico donde ya no hay conflictos solo existe

afrontar la realidad por difícil que sea sin autoengaños es la obligación de los políticos responsables lo demás es llevar los argumentos a un racionamiento

creo que es momento de poner orden de no agitar de forma irresponsable las aguas tampoco aquí en el país vasco no vaya a ser que su partido

pero sobre todo no volvamos al camino de la inestabilidad política de la incertidumbre y de la división que solo se traducen empobrecimiento económico y social yo soy consciente de sus aspiraciones soberanistas y desde el ejercicio de mi responsabilidad las combatiré políticamente pero por el interés de todos los vascos

termina vulnerando los derechos individuales de sus ciudadanos y confío en que ustedes

que nos separan de los más extremistas hoy ha querido concretar aquí

un estado confederal yo creo que es una novedad porque el señor ortuzar en el aberri eguna nos dijo que íbamos a ser como gibraltar y eso que es una colonia

que debe ser la única en el mundo y en los tiempos del lehendakari ibarretxe aspirábamos a convertirnos en un estado libre y asociado como puerto rico no pude sorprenderle que nos parezca

que es lo que quieren que seamos las bases sin embargo son siempre las mismas

dotada de un poder constituyente a la que hay que reconocer un derecho de autodeterminación o de secesión bilateral que eso sí dice usted que utilizaría para confederarse con el resto de españa solo que por el camino de salir adelante su última idea

habría dejado de existir porque el único camino legal para que su ensoñación se haga realidad es que los españoles decidan liquidar su constitución y dar por finalizada su convivencia después de quinientos años

que españa se suicide pero en un suicidio pactado desde el diálogo su propuesta tiene graves problemas desde todos los puntos de vista ancla el supuesto poder constituyente de la nación vasca en la disposición adicional primera de la constitución

primero porque hay que leer entera la constitución desde el preámbulo yo le recomiendo que repase por ejemplo los artículos uno y dos

y que corresponden a los territorios históricos es decir álava bizkaia y gipuzkoa que no sé tampoco entonces si en este supuesto tienen derecho individualizado a decidir o no y por qué no lo tienen

a través de un estatuto de autonomía como hace el estatuto de autonomía

por supuesto el nuevo estatus que pretenden conseguir de esta manera requiere cambiar las normas de la unión europea el acervo comunitario y aprobar una nueva constitución en lo que quede de españa posteriormente como estado confederado dispondríamos de poder judicial propio pase foral

las pensiones y las inversiones en infraestructuras sinceramente

y me parece que nos puede meter en un lio tremendo precisamente ahora que las cosas van bien sabe el señor lehendakari cuantos vascos a fecha de hoy

y bajando la sociedad vasca no quiere aventuras todavía recuerda con amargura la fractura que generó la última que ustedes impulsaron porque lo peor no es eso

pero no se sabe cómo terminan el señor mas empezó pidiendo un concierto económico

dividiendo a la sociedad catalana y despreciando la leyes se lo digo muy en serio

no se lo merecen ni los vascos ni el conjunto de los españoles

señor lehendakari ha sido precisamente con el estatuto de gernika que es la mayor expresión de acuerdo entre vascos

cuando euskadi ha alcanzado sus mayores cotas de progreso y bienestar ustedes lo dan por superado utilizando como argumento las supuestas transferencias pendientes

sirve para darnos cuenta de que existe un problema de garantías insuficiente

que atribuye a euskadi el estatuto esto lo que viene a decir es que las transferencias es un problema menor porque lo verdaderamente importante para ustedes

político en cualquier caso si ustedes mañana van a presentar ese documento tiempo tendremos de debatirlo en esta cámara lo que no puede hacernos creer es que el estatuto

o de bilbao que son competencia exclusiva del estado y lo que no conviene olvidar también que es que incluso en el ámbito de las competencias exclusivas del estado se producen con normalidad encomiendas de gestión para garantizar la colaboración de su gobierno que por tanto la colaboración de un estado moderno entre gobierno y administraciones que se superponen

al ciudadano señor lehendakari durante cuarenta años la violencia terrorista de eta ha asolado el país vasco causando empobrecimiento dolor y miedo y amenazando la libertad y la convivencia lo que buscaba eta y sus apoyos era imponer una suerte de nacionalismo forzoso al conjunto de los vascos

parece una locura pero en nombre de esa locura se ha asesinado

y extorsionado al conjunto de los vascos hoy los apoyos de eta justifican ese pasado de terror y siguen pretendiendo imponer un modelo autoritario a la sociedad han tenido que renunciar a la violencia terrorista porque han sido derrotados por la democracia y por el estado de derecho

en este mismo parlamento se facilitan herramientas para la defensa de su causa a través de una ponencia que lejos de buscar la deslegitimación del terrorismo se pone al servicio de quienes persiguen crear ese falso contexto del conflicto que justifique la historia criminal

vemos a veces a su gobierno más preocupado por el acercamiento de presos que por buscar un compromiso para que colaboren

todavía sin resolver promueven de forma deliberada la equidistancia entre violencias la equiparación entre víctimas en una estrategia que busca introducir a nuestra sociedad

sobre la trayectoria criminal de eta quiero decirle que desde el partido popular vamos a seguir ejerciendo la responsabilidad

porque nos concierne en primera persona de trabajar

y que ponga en el centro a las víctimas del terrorismo con especial preocupación

porque revela la intensa pedagogía que queda por hacer todavía en colegios e institutos vascos y especialmente grave nos parece que menores participen en los actos de homenaje y bienvenida a los presos de eta donde en muchas ocasiones

ante la indiferencia del gobierno deben hacer una reflexión señor lehendakari

cuando existe un grupo en esta cámara incapaz de condenar la trayectoria criminal de eta creo que después de cuarenta años de terrorismo

el reto estratégico de los vascos está en recuperar las oportunidades que la violencia nos arrebató en términos éticos

ahora podemos fortalecer una verdadera sociedad abierta modelo de convivencia cohesión social y de progreso donde no se pretenda sustituir las iniciativas de la sociedad

que busca la autonomía personal a través del empleo y favorece el emprendimiento el país vasco

menos intervencionismo menos clientelas más empleos y menos subsidios necesita un entorno abierto y atractivo para competir con éxito

nos contaba que el capital total del país vasco ha reducido su participación del conjunto español desde principios de siglo uno de los mayores descensos relativos entre las comunidades autónomas euskadi tiene una buena posición

y además ahora estamos creciendo y estamos creando empleo pero su posición relativa ha empeorado si se mira con perspectiva histórica y se analiza también la capacidad para la atracción de inversiones

el peor comportamiento ha sido en el sector industrial y en la construcción el sector industrial

pues ha pasado del veintinueve coma siete del pib en dos mil ocho al veintitrés coma tres en el primer trimestre de dos mil diecisiete sé que su objetivo es llevarlo al dos mil veinticinco que no se pueden

recuperar las posiciones que ya hemos perdido usted mismo en el arranque del curso político

de que hay treinta y seis empresas industriales en situación de riesgo y que peligran seis mil empleos estamos todavía esperando que alguien venga a contárnoslo al parlamento y que nos lo cuente

cómo va a crear un entorno verdaderamente competitivo para nuestras empresas está por ejemplo dispuesto

otros datos significativos ilustran también las oportunidades que estamos perdiendo nuestro crecimiento es fuerte

del de la media de españa el pasado año y once comunidades autónomas crecieron más que nosotros

que tardarán en ser recuperadas al ritmo actual de crecimiento y con una tasa de emprendizaje que es inferior a otras comunidades

que en el año dos mil ocho y nuestra tasa de desempleo que se reduce

que el nacional cae también por el efecto de la reducción de nuestra población activa de hecho nuestra población inactiva ha aumentado y representa hoy ya el cuarenta y cuatro por ciento de las personas adultas lo que da muestra del grave problema de envejecimiento hizo alusión dice su señoría que conoce los problemas

no me extraña nada porque vienen siendo los mismos problemas que cuando tomó posesión en el año dos mil doce de lo que no estamos tan seguros es de que sepa cómo arreglarlos

referirme a algún asunto primero en la educación y usted ha reconocido los datos del informe pisa

las políticas educativas no han funcionado son los peores resultados de nuestra historia encabezamos el gasto público por alumno pero tenemos

en el ranking educativo ante el suspenso de nuestro modelo educativo sorprendió que su gobierno reaccionara trasladando la responsabilidad a la comunidad docente y mostrándose incapaz de ofrecer un diagnóstico fiable sobre los motivos del fracaso

en el país vasco se ha relegado en demasiadas ocasiones a un segundo plano la apuesta por la excelencia educativa para priorizar objetivos estratégicos para el nacionalismo hablemos del plurilingüismo porque ha hecho usted también relación solo un trece por ciento de los profesores vascos

y eso que el nivel que se exige que es el be dos es inferior al que se pide para enseñar euskera que es el ce uno porque en ese caso el porcentaje de profesores que están cualificados desciende al ocho por ciento por lo tanto vamos muy mal si queremos acercarnos

dos mil veinte queremos acreditar para poder enseñar en lengua extranjera y este es un problema serio de equidad porque no todos tienen los medios para garantizar

usted ha citado este problema pero no ha dado con la solución

porque por ponerle un ejemplo de las setecientos cuarenta plazas para profesores en la oferta pública de empleo de este año dos mil diecisiete setecientos cuarenta plazas

se pide el inglés por tanto no parece que vayamos a disponer de medios para poder llevar adelante

si hablamos de las políticas activas de empleo y de lanbide el fracaso también es evidente en los dos aspectos de su gestión por un lado el sistema

de ayudas sin ofrecerles oportunidades de acceder a un empleo el año pasado lanbide intervino apenas en el dos coma cinco de las ofertas de trabajo registradas en euskadi que es la mitad del objetivo del cinco por ciento que se habían marcado ustedes

legislatura y en la gestión de las ayudas sociales que tiene un presupuesto que ya supera los quinientos millónes de euros

que a pesar de que estamos en una situación de repunte económico pues apenas desciende se viene manteniendo es el que más evidencia las carencias de nuestro modelo de protección nosotros somos solidarios pero demandamos que el esfuerzo se gestione de manera justa responsable y sostenible en los últimos tres años se han producido cobros indebidos por valor de ciento treinta y dos millónes de euros hemos conocido alarmantes casos de fraude tramas que falsifican pasaportes para estafar y cobrar la rgi perceptores de esta ayuda acusados de tráfico de drogas

en definitiva la ausencia de mecanismos efectivos de control provoca abusos en el sistema y alarma en los ciudadanos

este problema negaron los fallos del sistema y vetaron incluso la posibilidad de que pudiera ser debatido aquí han planteado ahora una propuesta de reforma que no sabemos cuándo van a implementar

ambigua y confusa incluso contiene medidas que suponen un retroceso y algunas otras medidas que ustedes aplican que son flores de un día y le pondré un ejemplo hace dos días conocimos que exigían ustedes el número de identificación de extranjeros a los ciudadanos de otros países

la medida ha durado apenas un mes este es el asunto grave que denota la falta de rumbo del departamento y la incapacidad para acometer

en ese caso disponer del requisito es fundamental para que las personas puedan regularizar su situación

o a los cursos de formación que se ofertan y cuando no se exige se les condena al subsidio permanente sin ofrecerles ninguna oportunidad que es exactamente lo contrario de lo que promueve lanbide y de lo que tendría que buscar nuestro sistema de protección echo de menos señor urkullu que su gobierno todavía entonces no haya puesto en marcha un marco de actuación global para gestionar las ayudas sociales

en la diputación de bizkaia que han impulsado un plan el diputado general ha asumido esa demanda

yo ya sé que usted no suele coincidir con el señor rementeria ni en política social ni en política fiscal y

que su gobierno hiciera lo mismo y tomara buena nota de las iniciativas de otros miembros de su partido nuestro sistema de protección social necesita una reforma integral ha insistido usted en un problema estructural que ya he mencionado que es el envejecimiento de nuestra comunidad con una de las mayores tasas de europa y que afecta

población activa sino también a la sostenibilidad de los servicios públicos hoy la población vasca es un veinticinco por ciento inferior que la de hace diez años además según estudios recientes la juventud vasca no identifica el matrimonio la pareja o los hijos como metas para ser feliz

capaz de enfrentarse a los desafíos del futuro por eso como no sabemos nada del cuarto plan de apoyo a las familias y no se ha concretado compromiso

a que lo haga lo ha fijado entre sus prioridades y ha dicho que era una de las causas del incremento del gasto y yo le pido que lo ponga en marcha lo antes posible

deseamos mantener la colaboración con su gobierno en los objetivos que podamos compartir usted sabe la importancia de tener presupuestos que es la principal herramienta económica de un gobierno

la estabilidad política que les permita funcionar tranquilos como para generar la certidumbre que consolida el crecimiento económico la creación de empleo y la recuperación social y yo quiero que a ustedes les vaya bien porque nunca me creen pero yo quiero que les vaya bien porque si a ustedes les va bien pues nos irá bien a todos

un acuerdo de gobierno que no le da la mayoría parlamentaria y le obliga a la búsqueda de socios para sacar adelante sus proyectos he reiterado

ocasiones quizás para algunos que nos podemos encontrar en la senda de la centralidad y siempre me encuentra

nosotros gracias a esa voluntad de acuerdo facilitamos la aprobación de los presupuestos vascos para este año y nos pareció que aquel era un acuerdo

fuimos capaces de converger en un modelo económico y social en el cauce de la moderación para apuntalar la estabilidad que necesita euskadi

no es todo lo que a nosotros nos hubiera gustado pero fue suficiente para tener un acuerdo y para evitar males mayores o situaciones de conflicto que bloquearan la acción del gobierno

que en la reforma fiscal que necesita euskadi no se subieran los impuestos

de los territorios que no se añadiera más carga fiscal a las familias y a las empresas que se fomentara el ahorro

que la mayor recaudación procediera del incremento de la actividad económica la reforma fiscal que está ahora en el debate público llega en un momento en que las haciendas vascas van a batir su récord histórico de recaudación

que el año pasado en dos mil dieciséis lo que significa que su gobierno tendrá setecientos millónes aproximadamente de euros más para gastar

porque no necesita pasar por esta cámara y por tanto yo creo que ese es un colchón y un alivio también para cumplir con sus objetivos de déficit usted va a tener más dinero este año

que iban a tener y en esas circunstancias yo le pregunto se plantea de verdad decir a todos los vascos que les van a subir los impuestos no

real que tenemos es que no llegamos a dar cobertura con los ingresos fiscales

de euskadi y que es ahí donde hay que actuar no atornillando más al contribuyente porque se sigue manteniendo el peso y el coste de la administración yo entiendo que hay razones de reparto entre las diferentes familias de su partido

y le pregunto dónde está su plan de racionalización

y de bajada consiguiente y solidaria de impuestos de sociedades y de la renta personal porque creemos que euskadi puede y debe permitirse este recorrido soy consciente

con su socio de gobierno porque primero tienen que llegar a un acuerdo entre ustedes mismos en este tema y también en la ley de aportaciones pero espero que acierten por el bien de todos termino ya señora presidenta el pasado curso político había una

dos grupos en la bancada de este parlamento apostaban

están aquí unos persiguen en nombre de los ciudadanos a anular su iniciativa y los otros plantean romper nuestros marcos de convivencia

creemos un error entregar políticas clave en la decisión de los partidos más extremistas

su oferta para los vascos más impuestos para cubrir más gasto público desde el partido popular del país vasco estamos plenamente convencidos de que solo un escenario de moderación y estabilidad proporciona los mimbres necesarios

y generando oportunidades por tanto yo lo que le quiero decir en esto lo que usted ha venido planteando

sopese bien las consecuencias de cambiar de compañero de viaje yo no puedo acompañarles en algunos viajes más bien aventuras que usted parece anticipar para el futuro

podrían ir bien hoy nos ha preocupado usted señor lehendakari porque ha venido precisamente hoy a la cámara a reivindicar el derecho de autodeterminación

nos preocupa esa atracción fatal que les empuja cada cierto tiempo a la posición de los más radicales

se pueda romper para embarcarnos en aventuras que no llevan a ninguna parte la vía vasca debe ser del diálogo de verdad la que hoy ha propuesto usted aquí suena más amable y parece

le pido una reflexión no echemos abajo lo que hemos construido y lo que podemos construir todavía queda mucho por hacer

y para que euskadi escale posiciones que lo puede hacer y le pido algo también muy en serio y ya con esto termino si ustedes son tan dialogantes como dicen ser y usted lo ha pregonado en esta tribuna se les llena la boca hablando de su gran capacidad

llevan meses sin llamarnos sin que tengamos noticias suyas ignoramos por dónde quieren discurrir

señor lehendakari no vaya a ser que cuando descuelgue el teléfono sea ya demasiado

sailburuok legebiltzarkideok agintariok lagunak arratsalde on los socialistas vascos afrontamos este nuevo curso

las certezas son que acertamos al decidir participar desde el principio de esta legislatura en las decisiones que permitan afrontar los retos pendientes en euskadi y que esa decisión socialista ha sido la llave para seguir ampliando acuerdos y desatascar conflictos porque el resto se inhibió de su responsabilidad desatendió lo que se nos pidió desde las urnas que fue el consenso pero nosotros optamos por desbloquear la gobernabilidad para ofrecer estabilidad a la ciudadanía

primero que nuestro trabajo sirva para que la mujer recupere el papel que le corresponde para que los jóvenes emprendan sus proyectos de vida

encuentren oportunidades para que los mayores tengan garantizada

y sobre todo para que nadie que lo necesite se quede sin una ayuda

que los socialistas nos volcaremos en forjar amplios y variados acuerdos

a los planes de empleo a la industrialización a la lucha contra la precariedad al reforzamiento de la rgi a la formación a todo lo que ya hemos puesto

y lo haremos sin exclusiones y sin vetos los socialistas queremos contar con las aportaciones de euskal herria bildu de elkarrekin podemos y del partido popular y nos esforzaremos

que la presencia socialista garantiza que todo lo que este gobierno haga responderá a las necesidades ciudadanas y a los principios de legalidad

certezas y seguridad y queremos que hoy quede más claro que nuca este mensaje queremos que hoy más que nunca

donde estemos los socialistas no les va a llevar nunca al abismo no lo vamos a hacer allí donde estemos los socialistas no se van a tomar decisiones ilegales pero tampoco se van a dejar pudrir los problemas allí donde estemos respuestas y soluciones y vamos a abrir las puertas al diálogo y vamos a vetar los vetos los socialistas vascos mostramos nuestra solidaridad con los catalanes con el conjunto de ellos con los nacionalistas y los no nacionalistas

porque los intereses electorales del partido popular en otros puntos de españa despreciaron la ambición de mejorar su autogobierno mediante el pacto entre diferentes porque conseguido ese objetivo electoral la mayoría absoluta del pp despreció ese sentimiento y porque durante cinco años

abusó para imponer recortes sociales pero abusó también para arrasar con el diálogo y el acuerdo como mecanismo para la resolución de conflictos y porque el independentismo

para quienes avasallan derechos y tienen problemas de corrupción en españa y en cataluña porque se ha quebrado la convivencia porque se está enfrentando a la ciudadanía y por todo eso

con los catalanes por todo eso por esas cosas que aquí en euskadi hemos sabido superar

definitivamente hicimos hace un año una apuesta de país una apuesta por el diálogo una apuesta por las soluciones una apuesta abierta a todos y a todas sin exclusiones sin vetos y sin humillaciones una apuesta para todos y para todas para los nacionalistas y para los no nacionalistas y de esa apuesta

hablar hoy de esa apuesta debemos hablar hoy de esa voluntad de diálogo y de acuerdo hoy más que nunca y ante la gravedad de lo que ocurre en cataluña queremos que los ciudadanos en euskadi sepan que nosotros sí les escuchamos que les atendemos

y que hay un gobierno y un parlamento centrados en su agenda y que hay una voluntad mayoritaria por fortalecer el autogobierno como la herramienta más útil para garantizar sus derechos como la mejor manera de organizar nuestra convivencia pactando entre diferentes por eso nos negamos a que ese debate necesario

hablemos de euskadi hoy hablemos de su día a día y sobre todo hablemos de su futuro hablemos de la política con mayúsculas de lo que opinamos unos de lo que opinan otros

precisamente por esta década en la que los catalanes no han tenido respuestas a sus problemas

quienes nos hemos comprometido en el gobierno sí las tenemos que vamos a practicar el mejor método que está a nuestro alcance que es el acuerdo abierto a todos

no es que el gobierno necesite los acuerdos para aprobar iniciativas es que los necesita el país para abordar las reformas es una convicción política y no queremos que nadie se quede en el rincón y este ha sido el esfuerzo del grupo parlamentario socialistas y va a seguir siéndolo y ya lo estamos haciendo

algo inminente vamos a defender en las cortes el fondo creado para las víctimas del amianto lo hemos debatido aquí lo hemos aprobado aquí y lo vamos a llevar para que se solucione allí donde existe la competencia y esto es lo que queremos hacer con el resto de asuntos de la agenda ciudadana que son muchos

esa mejora de la economía para eso nos pusimos como primer objetivo de este mandato el programa marco de empleo y es lo que ofrecemos a los trabajadores de empresas en dificultades

que sepan que nuestra preocupación no es nueva que nuestra primera iniciativa de la legislatura fue culminar los trabajos para la revitalización de la margen izquierda zona minera y oarsoaldea que no queremos demorar más esas propuestas

como queremos sumar distintos planes para la dinamización económica y social de otras zonas de nuestro país

el ejemplo más reciente es el nuevo parque tecnológico en abanto o los planes que se trabajan ya para las encartaciones de ahí deben salir nuevas oportunidades de empleo de ahí debe salir la reducción del paro de ahí debe salir que los trabajadores accedan a puestos de trabajo de calidad

en euskadi sus instituciones todas nos estamos volcando con ese objetivo también este parlamento que todos nos volcamos en perfeccionar

porque esa ley permitirá adaptar a nuestros trabajadores a las nuevas necesidades económicas a la revolución tecnológica estamos poniendo las bases de la recuperación

polémicas como la del turismo que no proponen un debate porque ya lo estábamos haciendo y con amplios consensos son polémicas que estallan por cuitas particulares y que olvidan a las cien mil personas que viven de ese sector y a las empresas que crean empleo

para hacer una ley que ofreciera todas las respuestas ante los retos del sector pero no pudo ser pero queremos que la oportunidad que nos ha dejado el fin de eta sea una palanca

de calidad en el empleo de calidad en los servicios que se prestan y de calidad social equilibrada y sostenible facilitar oportunidades de empleo y atajar la precariedad

es exprimir nuestras competencias para hacerlo posible y es lo que estamos haciendo con un plan de inspección que pretende convertir combatir el fraude laboral

han conseguido regularizar su situación laboral como es necesario regularizar y estabilizar el empleo público

ahora en todas las administraciones vascas se abre una oportunidad para que se completen plantillas

y sobre todo se estabilicen a través de las diversas ofertas de empleo en marcha ese esfuerzo en lo público debe venir también acompañado de un esfuerzo en el sector privado los trabajadores y trabajadoras vascas tienen que sentir en sus bolsillos la mejora de la economía hoy insistimos en el acuerdo que alcanzamos en mayo con euskal herria bildu reclamando una subida de salarios dentro del ámbito de la negociación colectiva pero mi partido no se queda en la mera declaración por eso proponemos para toda españa un pacto de rentas que rompa de una vez la dinámica de bajos salarios y trabajadores pobres

tendremos que tomar posición todos porque todos los que nos sentamos aquí tenemos representación en las cortes aquí en lo que nos toca abriendo caminos y un buen paso fue el acuerdo interprofesional de enero como lo es la recuperación de la mesa de diálogo social un foro donde acordar con empresarios y sindicatos las medidas con la que queremos poner a euskadi en el siglo veintiuno en desarrollo económico y en protección de derechos laborales

debemos propiciar ese diálogo para que los trabajadores que han sufrido especialmente en despidos y salarios la larga crisis participen de esa mejora económica corresponde a los agentes la negociación colectiva y nos corresponde a las instituciones generar el marco

esos acuerdos y cuando hablamos de derechos laborales pensamos especialmente en las mujeres porque todavía no hemos conseguido corregir la gran brecha salarial

y eso es algo profundamente injusto pero además su plena incorporación en condiciones de igualdad en la sala de máquinas de la economía será un factor de competitividad es un inmenso capital humano que esta sociedad no se puede permitir el lujo de desaprovechar a su plena incorporación debe sumarse también el compromiso de los hombres de la conciliación familiar esta euskadi envejecida

y que los padres y madres tengan los hijos que deseen sin temor a perder su empleo ni su bienestar y para ellos estamos extendiendo el sistema público de servicios sociales que abre además la puerta a nuevos empleos pero también es algo que incide en la igualdad entre hombres y mujeres

a su desarrollo personal y profesional iguales derechos iguales responsabilidades y quiero recordar en este punto a todas las mujeres asesinadas

deberemos trabajar en la ley comprometida para esta legislatura que parte de unos consensos básicos alcanzados en este parlamento ellas deben saber que seguiremos esforzándonos en que todas sean realmente libres y por eso creemos que debemos profundizar en la igualdad

expresamente el acuerdo alcanzado en el último pleno del pasado curso

la necesidad de reforzar nuestro sistema de protección y ofrecer oportunidades a quienes están atascados en la ayudas

esperamos que el partido popular aleje de una vez por todas

que tanto dicen disgustarle en otros y que asuma esa misma vocación el resultado no debe satisfacer plenamente a ningún partido debe satisfacer las necesidades de quienes no pueden subsistir con sus propios recursos así se lo he venido transmitiendo a todos los colectivos sociales con los que me vengo reuniendo para abrir el acuerdo

nos define como sociedad queremos seguir siendo un referente porque ninguna otra comunidad que ha realizado un esfuerzo en rentas mínimas llegan aún a donde estamos nosotros los socialistas sabemos lo que ha costado construir este modelo porque hemos estado en todos los acuerdos que lo han hecho posible a pesar de sus fallas es el mejor de nuestro entorno y lo ha sido por una vocación social y por amplios consensos y por ahí queremos guiar la reforma y también queremos estar orgullosos de nuestro modelo ambiental este verano hemos logrado el cierre definitivo de garoña mi grupo en el arranque de esta legislatura trajo de nuevo esta cuestión

ha desistido no lo ha hecho mirando a los ciudadanos ni su seguridad ni pensando en el modelo energético que necesitamos lo ha hecho solo por sus propias necesidades

energética que las centrales nucleares dejen paso a sistemas de producción más eficientes y seguros y en lo que nos compete vamos a reordenar nuestra normativa de protección de la naturaleza y de medio ambiente vamos a integrarlas en un concepto más amplio el de la lucha contra el cambio climático una lucha que es también una ventana de oportunidad para nuevos empleos para empleos verdes de regeneración en innovación

como lo es la cohesión social una cohesión que avanza desde que conquistamos el derecho a la vivienda en este año y medio un millar de familias ya han accedido a un techo bajo el que vivir y se ha informado a otras tres mil familias de que cumplen los requisitos para acceder

sin recortes para lograr estos y otros objetivos necesitamos recursos y para eso queremos los impuestos

qué servicios queremos tener cómo los podemos pagar que pague todo el mundo y que pague más quien más tiene

para garantizar la redistribución de la riqueza de forma justa por eso nos negamos a los debates simplistas sobre subir o bajar impuestos que tanto entretienen a otros

reclaman rebajas fiscales que rebajan derechos sociales y oportunidades de crecimiento hace tres años conseguimos culminar una reforma que veníamos tiempo reclamando la apuesta que impulsamos lideramos y acordamos está dando sus frutos primero conseguimos frenar el vaciamiento de las arcas

pero teníamos la mirada puesta en el medio plazo y lo estamos viendo ya en este ejercicio y con el despegue de la economía vasca y con mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal comprobaremos cómo se despliegan todos los efectos de aquella reforma esa es la política que nos interesa

a los retos de la globalización la revolución tecnológica y el envejecimiento retos ante los que euskadi no puede permitirse entretenimientos

un modelo educativo que precisa de un pacto renovado con la escuela pública como eje central de la igualdad de nuestros niños y niñas que es la mejor base de la igualdad del futuro

pero también a los retos de los nuevos terrorismos un modelo de radiotelevisión pública en el que nadie se sienta excluido con una gobernanza más transparente y menos politizada un modelo con raíces que no queremos arrancar para volver a plantar un modelo que sufre desgaste de materiales por el uso intensivo y que tiene que ponerse al día

cimientos sólidos que solo son posibles con amplios consensos ayer en la ponencia de autogobierno

hemos escuchado nuevas voces en favor del reforzamiento social de nuestro autogobierno para que sea un instrumento aún más eficaz y más útil para resolver las necesidades de los ciudadanos y no para crearles nuevos problemas es el foco que hemos querido poner desde la pasada legislatura y así lo registramos en esta cámara hace ahora veinte meses

pero el tiempo ha venido dándonos la razón vivimos momentos convulsos

y la garantía de la pluralidad hoy mismo están en juego los derechos civiles y sociales de los catalanes nos sentimos cerca de ellos porque euskadi y cataluña

y que hemos compartido nuestra historia en el proyecto conjunto de españa aquí nos ha costado entenderlo ha habido incluso quien ha matado por no entenderlo y hemos conseguido esa convivencia y lehendakari usted lo sabe sabe que los socialistas estamos en el gobierno con esa convicción que no estamos por un reparto

nos hemos hecho corresponsables de una euskadi en la que convivamos juntos

del futuro y no queremos que nadie eche ese esfuerzo por la borda y para eso nos ha hecho falta mucho diálogo y es lo que reclamamos para cataluña diálogo acuerdo garantía de pluralidad y ley porque la ley es imprescindible pero sabemos que el código penal

hace falta política con mayúsculas y es posible hacerlo en las cortes generales aquí en esta cámara ha sido habitual solidarizarse con una parte de cataluña no con cataluña solo con una parte no con las instituciones catalanas porque no ha habido ni atisbo de solidarizarse con los alcaldes perseguidos por cumplir la única legislación en vigor aunque no guste la única que ahora mismo

y nos hemos encontrado solos abogando por una ventana al diálogo y la reforma constitucional hoy la reivindicamos con más fuerza si cabe e invitamos a todos a participar de la solución pero además puede abrirse una nueva oportunidad para nosotros para el autogobierno vasco ahí es donde pueden encajarse

que el lehendakari ha puesto sobre la mesa esta mañana en una reforma constitucional previa otras habría que limarlas y acordarlas usted sabe las discrepancias que tenemos

fuera del gobierno por eso decidimos que el debate residenciara en este parlamento y que aquí fuera donde nos pusiéramos de acuerdo y le invito a remitirlas junto a las que ya hemos hechos los grupo las analizaremos dejemos trabajar

lo que acordemos deberá responder al ordenamiento vigente los socialistas nos ratificamos en lo que registramos hace veinte meses reiteramos una reforma

estatutaria que nos defina como comunidad con derechos y obligaciones que es lo que nos confiere la condición de ciudadanos vascos

la pluralidad de nuestra sociedad como nuestras singularidades y que blinde los derechos sociales que hemos ido desarrollando sin necesidad de transferencias como la renta de garantía de ingresos o el derecho a la vivienda y definimos para qué queremos actualizar el autogobierno

para el progreso y el bienestar de los vascos para qué queremos la transferencia de prisiones para cumplir lo que prevé la constitución en cuanto a resocialización

para ser corresponsables con un sistema público de pensiones sin romper el sistema unitario que es lo que dice la ley como nos creemos el estatuto y la constitución

sin perjuicio de sus modificaciones y creemos que como más se legitiman el estatuto y la constitución es cumpliéndolos esperamos que elkarrekin podemos consiga definir su idea de país e incorpore sus aportaciones a las del resto a partir de ahí debemos dar cauce

a los planteamientos de cada cual y el resultado queremos que sea lo más amplio posible los socialistas estuvimos en la transversalidad del treinta y seis y en la del setenta y nueve estaremos en la que venga siempre que como las anteriores tenga vocación social y cumpla los procedimientos establecidos en cualquier caso

no nos devolverá a abismos a los que se asomó euskadi hace una década tenemos esa certeza porque estamos los socialistas y donde estemos los socialistas no se tomará

hemos hecho una apuesta inequívoca por la convivencia y la pluralidad y la vamos a hacer valer allá donde estemos los socialistas queremos que los vascos voten un estatuto renovado en esta legislatura en un referéndum legal un estatuto actualizado que refuerce ese proyecto en el que hoy una amplia mayoría se reconoce

orgulloso de sus servicios públicos de los derechos conquistados para todos y de la solidaridad un espacio de progreso conjunto de crecimiento económico con recuperación social

no se trata de hacer un nuevo estatuto que sea socialista ni del pnv ni de eh bildu ni de podemos ni del partido popular se trata de actualizar un estatuto en el que nadie se sienta excluido vote a quien vote

a esa tarea común a quienes no quisieron estar hace cuatro décadas a la derecha más identificada con españa y a los independentistas ya tendremos oportunidad

lo que el grupo socialista propone es que todos pidamos a la vez la confianza a los vascos en un acuerdo para que sus derechos sociales el crecimiento del país y la pluralidad queden blindados en este espacio de convivencia al menos por otras cuatro décadas un espacio de convivencia en el que nadie se sienta amenazado y que no olvide por qué en este país se mató

y discreción la ponencia de memoria y convivencia se presenta como una nueva oportunidad de trenzar confianzas y abordar las cuestiones pendientes

sean las víctimas las que requieren aun reparación y verdad algunos se empeñan en querer asentar un relato falso pero los socialistas no lo vamos a admitir

las víctimas del terrorismo fueron son y serán palanca de todas las políticas públicas en materia de memoria y convivencia y lo seguirán siendo en todo lo que nos queda por hacer

de que así sea por ello mi grupo invita de nuevo al partido popular a participar en ese foro

y dejemos la polémica pública permanente porque es absolutamente inaceptable

se haya acusado de no querer la paz a partidos que han sufrido el terrorismo

la vuelta a las pintadas insultantes y a los homenajes que humillan a quienes han padecido a eta y es absolutamente inaceptable que se revivan fantasmas de traición a las víctimas

que eta ha vencido o que tiene todavía algún atisbo de vencer aquí había una banda que mataba para imponer

dejó de matar sin una sola cesión y dejó de matar gracias a la acción policial la judicial y la resistencia cívica de quienes nos negamos a ser expulsados de nuestra tierra esa es

la que ha conducido al desistimiento de eta porque no pudo vencer al estado de derecho eta denbora honetan eta behartu dugu bere menpe zituen armez libratzera

gogoz kontra y no se trata solo de emplazar al gobierno de españa que es el que tiene las competencias en política penitenciaria se trata de emplazarnos a todos a disipar recelos trabajar conjuntamente y ver como desde la ley ofrecemos fórmulas que permitan esa resocialización que prevé la constitución este parlamento puede allanar ese camino cómo hay que despejar las vías de reparación también a las víctimas de abusos policiales

amparadas en la excusa de la existencia de eta y una de las mayores fortalezas para un sistema democrático está en su capacidad de reparar esas heridas no está en nuestra mano impartir justicia

en las víctimas quienes compartimos principios éticos deberíamos compartir también la necesidad de esa reparación no hay excusa para que los poderes públicos se inhiban de su responsabilidad de amparo no es excusa que haya en esta cámara quien hable de forma descarnada sobre esos abusos policiales

no más excusas estas son las cuestiones en las que el grupo socialista quiere centrar sus esfuerzos en este nuevo curso político sin convocatorias electorales por delante es una gran oportunidad para resolver tareas que habíamos dejado pendientes en el pasado y que van a requerir esfuerzos de todos sin excepción

la ciudadanía quienes nos votan a todos quieren que volquemos nuestro trabajo y que lo hagamos con consensos amplios para que nadie se sienta excluido

sin conceder a nadie la capacidad de actuar sin los demás apelándonos a todos a buscar los espacios de encuentro es lo que los socialistas decidimos hacer

de país que creemos que ha sido un acierto y hoy vemos con más claridad ese acierto hace un año los ciudadanos nos dieron a cada partido una llave

esta decisión política que el pnv decidió compartir ha abierto a su vez otras puertas que parecían atascadas

que permiten consolidar el concierto y el cupo cubrir todos los puestos de la ertzaintza culminar nuestras infraestructuras ha sido más necesidad que virtud por parte del ejecutivo de rajoy pero creemos

tiene mucho que ver con nuestra apuesta por la estabilidad

algunos no hubiéramos entendido lo que querían los ciudadanos no estaríamos hoy aquí si los socialistas no nos hubiesemos hecho corresponsables del gobierno de euskadi tendríamos dudas dudaríamos si de nuevo nos arrastraríamos por el despeñadero del desacuerdo y del enfrentamiento pero no dudamos

no va a ocurrir ahora queremos ensanchar el espacio del acuerdo sin vetos queremos compartir decisiones que sean útiles a los nacionalistas y a los no nacionalistas

social y de convivencia para las futuras generaciones ese es nuestro desafío y tenemos que empezarlo en este curso político eskerrik asko eskerrik asko

arratsalde on denoi antes de comenzar quisiera invitarles a asistir este domingo

en defensa de la democracia y los derechos civiles convocada por nuestro grupo confederal en el congreso porque entendemos que el partido popular ha traspasado ya todas las líneas rojas creando un auténtico estado de excepción

ante problemas políticos no se puede responder con autoritarismo con detenciones y mucho menos con prohibición de debates públicos yo hoy no puedo callar ante el atropello descomunal que está cometiendo en nuestra opinión el gobierno de mariano rajoy y por eso acudiré el domingo a zaragoza a defender la búsqueda de soluciones políticas frente a la sinrazón del bunker del partido popular

en izquierda unida dicho esto y volviendo a euskadi

un año después constatamos que las políticas que se han venido realizando han sido sino las mismas

los casos de empresas en crisis que hemos conocido este verano y que a ustedes les parecen excepciones son en nuestra opinión consecuencia de la política del gobierno cuyo resultado está siendo la importantísima pérdida del peso de nuestra industria

mucho más precarias tenemos en estos momentos

o la naval cuyos trabajadores están hoy hoy mismo en pie de guerra defendiendo mucho más que sus propios puestos de trabajo

son imperdonables porque se trata de empresas con participación pública y el gobierno mientras tanto las estaba viendo venir

ha seguido aumentando un año después de la constitución de este gobierno precariedad especialmente lacerante en las condiciones de trabajo temporalidad jornadas parciales involuntarias horas extras ilegales y no retribuidas

son alarmantes nada de esto en su discurso de esta mañana no se ha acordado usted tampoco de quien protagoniza el ochenta por ciento del trabajo parcial

y las pensiones más precarias las mujeres el conflicto de las trabajadoras de las residencias muestra la mayor crudeza con la que actúa la precariedad laboral sobre las mujeres los trabajos más feminizados sufren peores condiciones laborales

lo dijo en este parlamento el consejo vasco de relaciones laborales

tenemos mayores de cincuenta y cinco años expulsados para siempre de la posibilidad de trabajar para vivir y jóvenes explotados con contratos basura que se perpetúan en el tiempo bajar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento en una legislatura

es en mi opinión sumamente fácil si se rebajan las condiciones laborales hasta los extremos que estamos conociendo nuestras condiciones cada vez más precarias quizás puedan permitirles a ustedes presentarse a las próximas elecciones

pero no podrán evitar un aumento de la conflictividad con una clase trabajadora que no llegue a fin de mes en el primer año de legislatura

y no a la realidad de nuestro país en euskadi el descontento de las trabajadoras y trabajadores públicos es también evidente en un año hemos visto importantes huelgas en sectores públicos como la educación transportes servicios de emergencia asistencia y muchos otros

al igual que hace un año seguimos sin compartir el modelo educativo de su gobierno que privilegia a la enseñanza privada respecto a una enseñanza pública con la mayor tasa de interinidad del estado seguimos sin compartir su modelo de externalizaciones de servicios públicos ni su modelo de fiscalidad

y no en las del capital políticas todas ellas que están necesitando del respaldo y del acuerdo del partido popular como hemos oído a cambio del apoyo

en el estado necesitamos eso estoy de acuerdo soluciones políticas a problemas políticos pero también en euskadi necesitamos otras políticas necesitamos políticas públicas contra la precariedad centradas en las necesidades de las personas

de la mano del partido popular eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari después de escucharle quién diría que en euskadi no hay problemas graves

pero la realidad es justo la contraria tenemos problemas vaya si los tenemos y su gobierno precisamente no está siendo un ejemplo en su actuación

un mal bombero que no se entera de los incendios y llega tarde me ha precedido en el turno de palabra mi compañero jon hernández

de las cuestiones relevantes en cuanto el empleo se refiere

difícilmente puede resolverlos le voy a leer una serie de titulares de la prensa vasca de las últimas semanas

cruda realidad que viven muchos vascos y vascas en su día a día el primero euskadi se enfrenta al otoño más caliente en lo laboral de los últimos años euskadi ha perdido

las afiliaciones de trabajadores en la seguridad social

en conjunto del estado euskadi cierra agosto con quinientos ochenta empresas menos

euskadi encabeza el aumento de despidos colectivos hasta junio mire la ciudadanía no nos ha traído hasta aquí para decir ni que todo es un desastre ni que la situación es catastrófica no es nuestra intención pero esa ciudadanía

que euskadi va de maravilla que sí que es cierto que las grandes cifras van bien pero hay una gran parte de este país que no está participando en esas buenas cifras egia da

no toman parte de estas cifras macro de esos buenos resultados las

del sector industrial que su propio gobierno reconoce que están en graves dificultades

de esa recuperación de la que usted ha sacado pecho muchas zonas de este país con tasas de paro muy por encima de la media de euskadi enkarterri el gran bilbao alto nervión oarsoaldea irún alto deba

artziniega ahora mismo el problema del paro en euskadi

con dos realidades y ritmos y velocidades diferentes la de los pueblos y ciudades que no van mal y aquellos en los que las cosas van peor

si no es que van a peor porque mientras su gobierno

de esas cifras macro el número de empresas en crisis

y hay miles de trabajadores y trabajadoras que no están viendo que

egunero pero qué es lo que hace su gobierno mientras tanto qué soluciones ofrece pues creo que la respuesta no es

y la señora tapia con las orejas gachas sabiendo que lo han hecho mal que lo han hecho muy mal

voy a hacer una cosa muy sencilla voy a repasar lo que han dicho ustedes lo que ha dicho usted y lo que ha dicho su gobierno sobre varias de estas empresas

el treinta de junio se presenta un pre concurso de acreedores y el tres de julio la señora tapia reconoce que no sabía nada de la situación de esta empresa y eso a pesar de que el gobierno vasco era uno de sus financiadores este doce de septiembre la señora tapia se reúne

tardó tres meses en recibirles y solo lo hizo cuando la empresa presentó un ere que ya era una realidad eso sí les ofreció medidas

este será un buen ejemplo de falta absoluta del control

ez du ezta informaziorik jasotzen ere enpresen inguruan el segundo caso el de la empresa cel un grupo empresarial rentable en el que el gobierno vasco poseía una participación del cuarenta por ciento

estando ustedes como estaban en el consejo de administración permitieron que se dejen de pagar

tampoco informaron a los trabajadores y las trabajadoras que el siete de junio se encuentran con un corte de luz y con la producción parada el veintisiete de abril ustedes se deshacen de su participación de la empresa y otra vez más no informan

que se justifique la decisión de retirarse del accionariado del gobierno vasco y usted y su gobierno han dado la callada por respuesta esa es su gestión

a centenares de trabajadores y trabajadoras de la comarca más castigada por el paro

y el tercer caso la naval que hoy tiene una importante manifestación vaya despropósito el que están protagonizando con la naval

vaya desastre de gestión que están llevando a cabo el siete de julio

había tiempo para solucionar la situación de la naval pero el ocho de julio esta misma persona ya decía

la naval en un día de repente dejaba de tener futuro el cuatro de agosto decía que los buques podían entregarse en tiempo

y hoy conocíamos la triste noticia de que un armador ha intentado llevarse al barco a las bravas qué visión de futuro el treinta de agosto cuando se veía venir el desastre

cómo podía haber llegado a este punto la naval una empresa que tenía carga de trabajo qué ha pasado

el señor urkullu remataba diciendo que ellos no hacen

curioso porque el ocho de septiembre en la reunión de su gobierno con el comité de empresa los trabajadores se quejan

de hecho la señora tapia no ahorra críticas a los trabajadores qué extraña forma de no hacer oídos sordos la que tiene su gobierno

si el treinta y uno de agosto el señor urkullu decía que iban a acompañar a la naval en la búsqueda de soluciones

otra vez nos encontramos con la señora tapia diciendo que no va a participar en ninguna mesa junto a accionistas y el gobierno central para buscar una solución el gobierno con el que usted hoy ha presumido de llegar a grandes acuerdos para quién son esos acuerdos porque desde luego para la naval está claro que no

decía usted que el preconcurso de acreedores no era su opción preferida

y el nueve ya se estaba hablando de un concurso ordenado de acreedores

iba a entrar en el capital social de la naval de repente sorpresa esta semana ya decían que no descartan entrar con una participación minoritaria algo que algunos ya comentaban hace tiempo de verdad se sienten orgullosos de su gestión

mirando a la cara a los trabajadores y a las trabajadoras que han estado en este parlamento escuchándoles esta mañana

sabe qué firmó el gobierno vasco con el comité de empresa de la naval en dos mil cuatro

pasaba necesariamente por formar parte del sector público empresarial y se comprometían a participar activamente en la gestión del astillero cumplió el gobierno vasco con la palabra sí o no la cumplió sí o no pero lo más triste sabe qué es

el partido socialista ha hecho de la naval de sestao y de la margen izquierda no vale señora mendia con llamar a ir a una manifestación en defensa de la naval como hicieron ayer

no se puede llamar a participar cuando ustedes están bien callados en sus consejerías sin decir nada sobre el desastre de gestión de su gobierno

explíquenos cómo puede ser que el gobierno gallego y que el gobierno andaluz estén apoyando a sus astilleros y el gobierno vasco no lo haga

es incompatible con la autocomplacencia y la soberbia con la que usted ha recitado aquí las cifras de empleo pib y demás con la enumeración de las decenas de planes

no se mide el número de planes número de planecitos se mide por la calidad humana en la escucha

se mide la capacidad para dar respuestas eficaces por anticiparse a los problemas

y por asumir la responsabilidad cuando se mete la pata y sabe lehendakari usted y su gobierno suspenden en todas estas asignaturas pero más aún se negaron como les pedimos en julio a hacer un pleno monográfico sobre empleo e industria

ni a hablar de cuatro punto cero ha hablado de una estrategia ris tres

no abandonen a los otros sectores industriales a los que más están sufriendo en la crisis

no pongan todos los huevos en el mismo cesto ahora voy a continuar

las políticas que nos ha expuesto qué decir de las políticas de igualdad y contra la violencia machista hoy señor lehendakari una vez más

solo una línea en el documento del líneas fundamentales que difundieron no hay ni una sola mención a los derechos de las mujeres o a la igualdad entre las mujeres y hombres y hoy usted

no ha dedicado ni un minuto de reloj a esta cuestión ni un minuto ha llegado pero sabe una cosa en nuestro país en su oasis vasco las mujeres son el setenta y cinco por ciento de las personas que trabajan sin contrato la renta media de las mujeres es un cuarenta por ciento más baja que la de los hombres y cada año se registran alrededor de cuatro mil denuncias por violencia machista en el hogar

y sin embargo el proyecto de ley de violencias machistas que ha citado

un solo euro asignado en su presupuesto no tiene ni un solo euro asignado nos ha quedado claro que los derechos de la mitad de la población de euskadi

un ejemplo reciente hoy este lehendakari es incapaz de plantarse ante un alcalde de su partido

a todas las instituciones en materia de desigualdad hoy también hemos tenido a la ertzaintza escoltando a un autobús tránsfobo en bilbao

pero sigamos qué decir de la contra reforma de la rgi

en el año dos mil once durante la irrelevante lehendakaritza del señor lópez se recortó un siete por ciento

cáritas llegó a señalar que en el peor momento de la crisis el gobierno vasco dejaba sin cobertura

según ustedes la economía se recupera según ustedes hemos vuelto a niveles previos a la crisis y sin embargo ese recorte de siete por ciento sigue sin revertirse

ha sido su gobierno el que ha desvinculado la cuantía del salario mínimo ha sido usted explíquenos lehendakari cómo se lucha contra la pobreza con prestaciones económicas que están por debajo del umbral de la pobreza y más aún

de culpar a los pobres de estigmatizar a las personas que necesitan apoyo de sus instituciones hablando a todas horas de un fraude que según ustedes

el señor rementeria ha empezado a tener un extraño parecido con el señor maroto tenga cuidado lehendakari no vaya a ser que la señora artolazabal acabe adelantando por la derecha a gemma zabaleta

es tan desastrosa que la mayor parte de quejas que recibe el ararteko tiene que ver con esa cuestión y las quejas y reclamaciones suben

una mala gestión que se ensaña básicamente con las mujeres de nuestra sociedad

se ensaña con el noventa y uno por ciento de esas viudas perceptoras de rgi

con una pensión tan baja que necesitan complementarla o con las doce mil doscientos cuarenta y dos personas que aunque trabajan

pero tranquilo hoy no le vamos a recordar las desafortunadas declaraciones de la señora artolazabal

euros hoy tampoco les vamos a ametrallar con decenas de datos que hablan de la pobreza de la ausencia de bienestar

no yo voy a traerles un dato que es esclarecedor como pocos es un dato poco frecuente pero que habla por sí mismo

hay una diferencia de cerca de diez años en la esperanza de vida

como que el nivel de renta condiciona el nivel de salud sino que esa euskadi dual la que sale de la crisis y va a toda velocidad

y es innegable y su gobierno además ahonda en esa lógica de desigualdad

la ahonda cuando recorta o no revierte los recortes en el sistema de protección social como la rgi cuando usted no hace una apuestas más clara por osakidetza o por la educación pública

al ámbito educativo nos sorprende mucho que en su discurso de hora y media no haya citado ni una sola vez a la educación pública

los datos hablan por sí solos desde dos mil nueve ha descendido el gasto público en educación

además la división en dos redes pretende ser vendida desde una idea de complementaridad

se está fomentando es una segregación social en función de las condiciones sociales económicas del alumnado y sus familias es necesario invertir más y mejor en la escuela pública

de la mano de la comunidad educativa un proyecto definido y claro para la escuela pública vasca porque es la escuela pública la única opción que puede asegurar la equidad y la cohesión social ha hablado de alcanzar un pacto educativo ahora bien el ejecutivo actual está dispuesto a corregir sus prioridades presupuestarias en la educación pública

tener menor nivel de estudios o ser desempleado de larga duración aumenta la posibilidad estadística de tener un peor estado de salud

de forma que sus trabajadores y trabajadoras tengan buenas condiciones laborales y sean reconocidos por su labor

con que en euskadi el veintisiete por ciento total del gasto sanitario sea privado porcentaje que además va aumentando durante estos años

qué se ha hecho en este aspecto nosotras en este comienzo de legislatura hemos registrado nueve iniciativas en materia de salud

podología salud mental rehabilitación a grupos sociales mal atendidos como las personas mayores

hemos traído los problemas laborales de los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias y hemos criticado los procesos externalización de hospitales como el de urduliz la mayor parte de estas propuestas ustedes las han tumbado

el partido popular ustedes se han negado a dar cobertura odontológica

a embarazadas o a mayores de sesenta y cinco años se han negado a mejorar la atención de podología a diabéticos o a personas mayores

he citado varias veces también al partido popular y creo que es importante que justo hoy hagamos memoria un repaso de la insensata aventura de su partido y de su gobierno en los últimos meses

que hubieran llegado a un acuerdo con el partido más corrupto de europa poco después se confirmó cuando su partido apoyó las cuentas de un gobierno asfixiado como el de rajoy

ustedes presumían de lo rentable que era ser el único sostén del gobierno del partido popular fíjese pedimos en este parlamento pedimos que se pronunciase

del gobierno de rajoy y esta cámara contra el criterio de su partido dijo que no a esos presupuestos pero a ustedes no les importó y siguieron pactando con el partido popular fíjese que pedimos la reprobación de rajoy y su gobierno por su corrupción estructural y también ocurrió

pero fíjese que a ustedes eso no les importó y siguieron jugueteando con el diablo fíjese que hasta hace escasas semanas no veían inconveniente en seguir llegando a acuerdos con rajoy a pesar de la situación en cataluña y ahora no lo ven tan posible

que pinta y manda más que nunca en la política vasca un gobierno en madrid indecentemente corrupto y que está limitando de una forma preocupante derechos fundamentales como el de reunión

y si todo esto pasa es por su abstención la del partido nacionalista vasco y la del partido socialista en la moción de censura a rajoy y su falta de escrúpulos a la hora

hoy toda esta crisis sin precedentes en los últimos cuarenta años se hubiera evitado si hubieran apoyado la moción de censura contra rajoy y es que hoy señor urkullu

cuanto menos curiosos habla de las transferencias pendientes de esas que efectivamente

pero que ustedes han aceptado durante décadas usar como moneda de cambio

si hoy el actual estatuto está sin completar y está devaluado políticamente no es exclusivamente por el centralismo de madrid que existe y es muy fuerte

cada vez que ustedes mercadeaban competencias o el cumplimiento del estatuto a cambio de presupuestos investiduras deterioraban el pacto social en torno al estatuto así que hoy no vale venir a esta cámara con un tono victimista es que ustedes este mismo mes de septiembre

y de la competencia en materia penitenciaria a cambio de apoyar los presupuestos generales del estado por lo tanto victimismo el justo

lo primero anunciamos que en este inicio de curso político vamos a sustanciar vamos a traer a esta cámara el debate

pero eso sí en una clave diferente a la suya nosotros porque es lo que se votó en mil novecientos setenta y nueve la ciudadanía vasca porque se trata de una competencia clave para mejorar la de nuestros presos comunes de los miles de reclusos comunes nosotros en clave institucional y buscando el acuerdo entre los partidos de esta cámara poniendo como condición

pero también le digo una cosa nuestro grupo no ha llegado a este parlamento a ajustar cuentas del pasado

y estamos dispuestos a llegar acuerdos sí

pero no para cualquier acuerdo ni cualquier estatuto larunbat honetan bilbon

horrelako gakoak ematen dira eta ematen ditugu será un texto que va muy en línea con lo que se ha podido escuchar

un texto pensado para transformar la realidad actual de la sociedad vasca en claves de más prosperidad

de mayor convivencia de más capacidad de decidir y más cercanía y transparencia en la gestión de las instituciones vascas una forma diferente de entender el autogobierno y de construir euskadi que no se miden ni a peso ni en número de competencias

y en la finalidad de cada actual y nueva competencia en cambio usted ha planteado el autogobierno únicamente como un proceso de construcción nacional

no tenemos inconveniente en decir que euskadi es una nación y que podemos aspirar a otro estatus político

es una herramienta para blindar nuestros derechos sociales es ante todo

usted ha hablado de que la vasca es una sociedad plural pero hoy usted solo ha pensado en la demanda en las demandas legítimas de una parte

de todos y todas las vascas y por último queremos dejar claro también que nos sumamos y pensamos

en que la situación en cataluña es grave e intolerable en que nuestra posición al respecto de este conflicto político siempre será

y el de solicitar más democracia más diálogo porque poco hay y acuerdo no a ninguna imposición no a ningún choque de trenes y desde luego no a ninguna vulneración
de los derechos fundamentales de la ciudadanía eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

herritarren erabakiaren alde euskal herria bildu coincide en la defensa de la democracia con el parlamento y el gobierno de cataluña con decenas de entidad culturales científicas deportivas profesionales empresariales y sindicales de cataluña

con los millónes de catalanas y catalanes que se resisten ante quienes pretenden robarles sus únicas armas su voz y su dignidad

o se está en la defensa de la democracia con el parlamento y el gobierno de cataluña con las entidades catalanas o se está con el gobierno y el estado español que pretenden liquidar las libertades civiles de los ciudadanos en un lado

en vez de invertir en investigación y desarrollo a nivel de europa invertimos más a nivel español

en estos momentos su gobierno está aplicando la lomce los resultados han evaluado negativamente sus políticas y tiene la comunidad educativa en la calle y yo creo que es el momento de reconocer que ha habido grandes errores

el número de profesorado interino que mantiene incide en esa calidad

la segregación escolar necesita medidas activas necesitamos un sistema que garantice la igualdad de oportunidades y tenemos graves lagunas

que responder en estos momentos nuestros impuestos pues nuestros impuestos efectivamente son casi calcados a los españoles nada que ver a los europeos

porque usted puede continuar con su marketing de las personas primero o euskadi auzolanean baina begira urkullu jauna duela

eta ez duzue bertako eredu sozio ekonomiko eta industriala defendatzeko pausurik eman hemos perdido muchos años y ahora mismo el índice de competitividad regional europeo quizás el índice que mejor mide la riqueza de nuestro país y el

de un total de doscientos sesenta y tres regiones europeas hace solo cuatro años estábamos en la posición ciento tres siempre ha sido una obsesión para mí la inversión en investigación y desarrollo y fíjese en dos mil diez estábamos en la posición ochenta y ocho que tampoco era una cosa para echar cohetes

no hará falta decir que la inversión en innovación hoy supone el empleo y el crecimiento de mañana baratza ongarritzea da

su gobierno fue elegido en noviembre del año pasado en álava gipuzkoa y bizkaia ese mes de noviembre había novecientos veintidós mil afiliados a la seguridad social en todos sus regímenes

y hablemos de los últimos datos de este año que son de agosto de dos mil diecisiete o sea

novecientos diecinueve mil afiliados menos con lo cual se han perdido

se han perdido diez empleos que son mujeres y hombres

a ustedes parece que les importa poco la precariedad

a maestras enfermeras médicas con un sueldo inferior al que cobraban hace diez años y sin devolverles todavía la totalidad de la paga extra que les quitaron hace cinco y ahora dicen que les van a subir el sueldo un uno por ciento ba jakingo duzue inflazio

pues el dinero está donde siempre en los bolsillos de los de siempre en aquellos

handia izango da espainiako estatua el estado español tiene tan claro su orden de prioridades que de un plumazo anteayer se cargó de facto incluso

hori da proposatzen diguzuna estatu libre bat da zuk gaur proposatzen diguzuna urkullu jauna lo que propone es que pasemos de un régimen de autonomía a un estado de soberanía que se relaciona con otros estados

o no usted cree de verdad que esto es posible con quienes mandan tropas a barcelona señor urkullu

y usted mismo ha dicho que el tribunal constitucional ha reconocido la importancia de los derechos históricos

reiteradamente una y otra vez y se lo voy a citar con una sentencia la propia actualización de los derechos históricos es consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema que posee la constitución norma a la que están sujetos todos los poderes del estado como constatamos en la misma sentencia la soberanía nacional de la que emanan todos los poderes del estado imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas

que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales y ello porque la constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas

y superiores a ella sino una forma de poder constituyente

sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores es decir derechos históricos sí pero sin perjuicio de la unidad de españa del artículo

con eso queda todo dicho eta esaten zenuen europar batasunaren anbitoan

horixe da que usted hablara de un estado independiente señor urkullu

gurea harreman bilaterala zela nos han tratado de convencer que sí que ustedes eran buenos negociadores pero vemos ahora que cataluña ha logrado reventar las costuras de un sistema que tiene gravísimas carencias democráticas que ha puesto sobre las cuerdas las estructuras del estado

mientras regala miles de millónes a la banca éramos muchos los que pensábamos que el rey de españa el estado español estaba desnudo y ha sido cataluña quien ha puesto de manifiesto

bi mila hamaseiko irailaren hogeian el pais egunkariaren azalean la independencia en el siglo veintiuno

egun hartan bertan aquel mismo día en una gran foto del mismo periódico veíamos al diputado del partido demócrata catalán y exconsejero de presidencia francesc homs

de noviembre del catorce luego lo inhabilitaron a pesar de ser un representante elegido por el pueblo

rajoy elogia el pacto y entendimiento con el país vasco frente al enfrentamiento antidemocrático de puigdemont eta

el pp aplaude la cita rajoy urkullu y la pone de ejemplo

y finalmente vuelve usted a elegir una fecha de máximo simbolismo el once de septiembre diada nacional de cataluña para descolgarse con aquello del respeto a la legalidad eso mientras uno millón de personas se manifestaba en barcelona con todas

haciendo amigos señor urkullu pero desde luego haciéndolos en madrid le aplaudieron a rabiar su intervención del día once y fíjese que parecía difícilmente superable pero el día catorce con el presidente puigdemont querellado la presidenta del parlamento querellada

imprentas y medios de comunicación registrados y cerrados el catorce de septiembre

y casualmente vuelve a acertar con el día porque es el mismo día que comienza la campaña electoral

contra la presidenta de la asociación de municipios por la independencia y además cierran sus

todas las garantías de este tipo de procesos en una democracia occidental y además una comisión de observadores internacionales encabezados por daan everts embajador de la organización para la seguridad y cooperación europea

civil de la otan en afganistán colaborador de la unión europea de las naciones unidad un diplomático de altísimo rango cuya opinión me va a permitir señor urkullu será

y ellos velarán porque el referéndum se celebre con todas las garantías mire lo único

sobra al referéndum catalán son las detenciones las amenazas las multas las inhabilitaciones y el terror que genera el estado español es lo único que le sobra el referéndum catalán batez ere oso larri iruditzen zait zure jokabide politikoki

dar oxigeno al partido popular es incompatible con defender la democracia

más gasolina al fuego pues mire sin oxigeno no hay fuego

no hay fuego y seamos honestos y reconozca de una vez por todas que usted no quiere la independencia para cataluña que le molesta que hayan llegado tan lejos porque

de explicar durante todos estos años que un pacto aquí que un arreglo allá que esto era lo mejor pues a lo mejor hay otras vías pueden existir otras vías si cataluña es independiente y se sienta en las naciones unidas y a nosotros nos sigue representando el señor rajoy

señoras y señores del gobierno se merecen un gobierno más ambicioso y no esta tristeza

en que han envuelto a este país rosa parks

del papa francisco dice que no hay mejor antídoto para los populismos

y cuando en un parlamento y en un país tenemos no desde antes de ayer no desde hace cinco años sino desde hace tres décadas un sistema que se ha ido aderezando que se ha ido mejorando y que cada vez es más justo

puede haber sitio para iniciativas o modificaciones pero dígame usted

en la que sus partidos o los correligionarios gobiernan se

como el que tiene la comunidad autónoma vasca o que hemos conseguido de común acuerdo también en navarra bildu podemos izquierda ezkerra y geroa bai dígame no hagamos demagogia

explicar el cómo se puede sostener con datos

diferente presión fiscal que se dice cuando los índices

sea de medición de desigualdad o de renta disponible resulta que nos sitúa en todos los puestos punteros egia da hor gertatzen dena

porque es evidente que lo que es de deducción lo que es desgravación

lo mismo que la presión fiscal del irpf si eliminamos las deducciones de vivienda

evidentemente la presión fiscal sube cuatro o cinco puntos de ahí la razón

en índices de desigualdad estamos entre los países con menor desigualdad de toda europa y del mundo y entre los países punteros también en renta disponible fiskalitate kontuekin

en este momento y en otros también pero voy a ser también perseverante

porque sinceramente creemos que en el tema de la

el pp tiene que ser un activo y no un pasivo tiene que ser un activo

yo creo que debieran participar siquiera por responsabilidad institucional digo responsabilidad institucional porque

tienen cosas que decir y que aportar y también nos tienen que ayudar a convencer al partido popular central para que haga posible otra política penitenciaria mire hay un dato

está diciendo cómo piensa el electorado del partido popular de aquí y creo que dista

mucho de las posiciones políticas que están gestionando ustedes lo digo así

no lo formulo como una necesidad imperiosa hago una reflexión política y creo

debiera ser un activo eta eh bildu baino

lo digo con absoluta claridad porque eso que se llama la revisión crítica del pasado nosotros lo décimos y lo formulamos como petición para poder edificar un futuro compartido en lo que es la acción política democrática y creemos que también podemos y debemos avanzar pasa gaitezen

onetara hombre el campo de juego es el estado español el ámbito de las decisiones

impedimentos o necesidad de acuerdos cabe preguntarse ha madurado democráticamente

una reforma de alcance ha madurado democráticamente se ha modernizado se ha adaptado a los nuevos tiempos está homologado

pues visto lo visto en cataluña no parece yo creo que ni ha avanzado ni democratizado ni modernizado el propio decía está semana la idea que parecen tener el gobierno español y el señor rajoy

no dejando votar es de la era pre democrática algo del pasado en españa creíamos que había avanzado

baina parlamentu honek esperientzia badauka de la reforma estatutaria

rechazada sin admitir siquiera a trámite la propuesta de reforma

restableciendo rescatando de nuevo el partido popular y el partido socialista el recurso previo de inconstitucionalidad para que

para que nada se escape es evidente que

desaparece el cauce democrático entonces lo que estamos planteando sabemos que es una empresa difícil complicada

decir hazlo tú y si vienes y fracasa ya veremos me tendrás que dar la razón inténtalo no vamos a compartir compartir qué tenemos que compartir cuando estamos hablando de principio democrático estamos hablando

estamos hablando de la obligación de negociar acordar los ajustes legales precisos necesarios

porque ese es el meollo del principio democrático aplicado en quebec canadá hay una legitimidad

y que obliga a la modificación de la legalidad siempre negociada

negociar y esto es importante visto lo de cataluña porque lo de cataluña también el relato comprimido te lleva a pensar que bueno estos pues se han vuelto locos y

intentando sacar adelante lo imposible no no negociar bajo la premisa del principio democrático excluye

la unilateralidad si se aplica el principio democrático queda fuera la unilateralidad la unilateralidad

porque la negación o negar o prohibir o anatematizar a lo que puede ser un acuerdo o esa aplicación de principio democrático abre la puerta a la unilateralidad y eso es lo que ha sucedido en cataluña

no ha habido posibilidad de negociación no es que se haya orillado se ha pisoteado el principio democrático

respeto a la pluralidad respeto a la pluralidad esto es diálogo negociación acuerdos con el máximo consenso si es posible

en ausencia de estos prevalece el principio de la mayoría democrática otra cosa es que el ánimo tiene que ser de buscar acuerdos y de consensos pero sin derecho a veto y evidentemente

la propuesta que el partido nacionalista vasco también depositó hace casi dos años iba a decir pero en enero

hablamos de un fondo de poder y hablamos de unos derechos derechos individuales sociales

que tienen que tener su proyección en el nuevo estatus y hablamos también de una consulta habilitante porque entendemos que sí puede ser el primer ejercicio de definición y de derecho a decidir de la ciudadanía vasca que puede

y que después pueda sancionar a través de una consulta habilitante el texto que se vaya a negociar y

habría que preguntarles si están dispuestos a admitir ese principio democrático

combinado con el principio de legalidad hau da guk presentatu duguna ahora quiénes hemos propuesto

básicamente ha sido el partido nacionalista vasco nosotros nosotros presentamos la propuesta eh bildu se incorpora al debate porque en dos mil cuatro también

pero no presentaron ninguna enmienda entonces había otra combinación estratégica y no tocaba pero bueno eso es pasado ahora se supone

va a haber una actualización de la propuesta registrada en enero del dieciséis también

el partido popular ya sabemos lo que propuso y

ha dado referencia idoia mendia y lander martínez ha adelantado que este sábado hay una presentación pública que después conoceremos bueno pues ahí nos vamos a ver

en una serie de principios que he citado principio democrático principio de legalidad evidente

estoy dispuesto a reconocer que euskadi es una nación hombre no sé qué es o es una nación o es una demostración o es una vejación o es un ejercicio de tolerancia pero bueno

pactamos el ejercicio de qué manera qué es lo que presentamos a la ciudadanía de qué manera puede participar plasmados todos esos derechos nosotros hacemos una apuesta decidida porque somos entendemos un pueblo mayor de edad que quiere

ser responsable de sus decisiones de las que afectan a sus ciudadanos

gestionar esa responsabilidad en todas las materias que afectan a la ciudadanía en el día a día y por supuesto también las decisiones que afectan al desarrollo político del pueblo vasco estamos hablando del pueblo vasco también de sociedad vasca pero quien tiene ese derecho a decidir

los sujetos políticos son esos salvo que haya una novedad eta hori da guk proposatzen duguna laburki esanda eta denbora aurrera doa y como lehendakari ha hecho también una aportación

alguno ha optado por la simple descalificación otros

no sé si quince o dieciocho preguntas respecto

la salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del estado confederal

nosotros entendemos el derecho a decidir como la obligación de proponer a tu ciudadanía a tus conciudadanos

que atendiendo a los condicionantes del presente sirva para superar los obstáculos que se nos presentan propuestas con itinerarios viables que existiendo voluntad política son factibles

propuesta desde ese principio democrático y además sobre las bases de la soberanía y la justicia social qué es lo que se está proponiendo en definitiva cuando estamos hablando de una confederación estamos hablando de estados que conservan su soberanía estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes hori da

eta klaro el planteamiento confederal lo que hace es

lo que no puede ser es que la pertenencia sea obligada

pero es que es un cambio de paradigma es pasar de eso de voy a acordar en españa voy a acordar con españa y tener un buen acuerdo de vecindad con unas leyes comunes

hasta los detractores de la fórmula confederal cuando menos reconocen que ese vínculo confederal existe aunque son restos de soberanía el concierto y el convenio que existe y el anclaje dónde está en los derechos históricos

después nos ha leído una sentencia hombre yo además de la sentencia tengo el texto que utilizó aguirre aguirre el lehendakari

por eh bildu que hace uso de una reflexión de alcibar que es el pseudónimo de rafael picavea un nacionalista

que decía y aguirre hace suyo fuero fuero quiere decir

facultad soberanía será foral todo aquello que el pueblo

por su voluntad sin que esté obligado a someterse

la esencia del fuero no está en la historia de su existencia

autodeterminación en todo tiempo lo que el pueblo quiera y lo que quiera hoy

sino todas aquellas que el pueblo vote con sujeción a su modalidad democrática esta es la interpretación que tenemos nosotros que evidentemente

si le décimos si es constitucional nos dirá que no el asunto es si hay voluntad

hay anclaje hace falta voluntad política por lo tanto cambio de paradigma de acordar en españa

y también hay que decirlo necesitamos estructuras de estado

y si la ciudadanía mayoritariamente precisa de estructuras de estado para autogobernarse

dónde está el problema que no es un capricho también creo que esta formulación sirve para salir de ese laberinto judicial y político en el que se ha convertido el estado de las autonomías porque las treinta y tantas pendientes ahí están en algún recodo en ese laberinto

vete a saber dónde pero se han perdido en el laberinto judicial y político hace falta

esa es la propuesta que se puede negociar o cuando menos se puede discutir

la perseverancia zergatik hori bertute bat da no es la tozudez es la perseverancia

intentar sacar adelante ese objetivo compartido eso merece todo el respeto y desde luego las gracias a esa mayoría que

se ha venido posicionando por el derecho a decidir de cataluña horregatik gure errekonozimendua porque aquí tenemos un problema y digo tenemos porque el partido popular

nosotros no es que

bien a ver

un relato que no se creen un relato que dice

por cierto todavía no cumplimentado ese es el único acuerdo vean ustedes las sesiones últimas del congreso de los diputados

los momentos o estados de necesidad del partido popular por cierto lander martínez usted aquí venga

y ustedes los de podemos tuvieron la oportunidad de que rajoy no fuera presidente votando a sánchez y no lo hicieron

no lo hicieron esa oportunidad no me la pase no me la traslade de responsabilidad y

en las que ustedes y nosotros hemos participado recientemente bien sean protestas o lo que fuere hemos participado por convencimiento y por coincidencia punto por cierto si eso es así no nos vengan preguntando todas las semanas a ver cómo vamos en política penitenciaria con el pp

si rompemos rompemos incluso para esas relaciones

haber si aflojamos a ver si tal txukun eta koherente izanda

eso es un futurible y por futurible

que es algo que no va a suceder salvo que se cambien las condiciones de presente

cambio de las condiciones del presente los presupuestos no se será una quimera

he escuchado del partido popular primero una reflexión en relación a lo que es la democracia representativa y una apelación a que yo tengo que elegir y

lo mismo me han dicho también otros portavoces no se quede usted con la exclusiva con respecto a cataluña

la posición que el lehendakari ha mantenido y la que mantiene el partido nacionalista vasco

a quien ha criticado incluso de ponerse del lado de los más intransigentes ha hecho una reflexión sobre lo que es el dialogo la negociación sobre lo que es el estado de derecho sobre si es posible hablar en democracia cumpliendo la legalidad

bien ha manifestado la voluntad del diálogo pero también la ha contrapuesto con la tesis del conflicto y volvemos otra vez a la tesis del conflicto y ha

en cuanto al nuevo estatus nos ha dicho que estamos confundidos o yo por lo menos puedo estar confundido lo ha mezclado nuevamente con el derecho de autodeterminación y ha mezclado nuevamente el derecho de autodeterminación o ha vinculado el derecho

con la secesión y eso le llevaba a una conclusión y es que lo que queremos es que españa se suicide bien ha hecho también usted una

ha vuelto usted sobre el estatuto diciendo que está superado el marco jurídico político y luego ya ha entrado en otro terreno como es el de la violencia terrorista

y la referencia a la ponencia de memoria con el acercamiento de presos la amnesia y el relato como elementos centrales en lo que ha sido su exposición con respecto a lo que parece ser que es el trabajo de la ponencia de memoria en cuanto al

usted se ha reivindicado que debería ser un modelo social más liberal el que debiéramos acometer con menos intervencionismo curiosamente en contraposición con otros grupos de la cámara y luego ya hemos entrado en el terreno del producto interior bruto del empleo de la fiscalidad del crecimiento comparado ha ofrecido usted una serie de datos para pasar posteriormente a lo que es educación pisa plurilingüismo equidad

lanbide lo ha tildado de fracaso ha entrado en el ámbito del marco de las ayudas sociales con una apelación también a lo que es el modelo

para ligarlo también con el envejecimiento de la población las políticas de ayudas a las familias y por último usted señor alonso

haciendo una constatación que yo esta misma mañana ya la he mencionado y es que no disponemos de mayoría y en ese sentido también lo ha vinculado con la reforma fiscal con las

tengo el documento de bases de lo que fue el acuerdo entre el partido popular y el partido nacionalista vasco y el partido socialista sobre lo que eran los presupuestos del año dos mil diecisiete y he abogado por una racionalización del gasto en un escenario de moderación y de estabilidad

ha empezado por una crítica a lo que es el gobierno español y su atropello descomunal no comparte las políticas del gobierno vasco y acusa al gobierno vasco de vivir con la influencia del partido popular ha entrado en el terreno de las empresas en crisis y ha dicho que son consecuencia de la política industrial de este gobierno la situación de las empresas en crisis

seguido con la precariedad la desigualdad de género las condiciones laborales las huelgas y por último ha abordado la cuestión de la educación

y en la externalización de servicios en general tanto en educación como también en el ámbito de la salud el señor lander

ha planteado la comparativa de zonas con problemas volvemos otra vez a una enumeración de las empresas en crisis además de lo que fue la referencia de las treinta y seis empresas en crisis a las que yo aludí a finales del mes de agosto ha mencionado a fagor edesa cel y la naval

como un relato de parte y poniendo además también lo que es el ejemplo de astilleros

los que afectan a galicia o andalucía lo ha mezclado también con la ris tres y el mensaje que nosotros tenemos de ris tres de especialización inteligente

la carencia de mi intervención en este ámbito la educación pública y la educación pública y la salud y en relación también a lo que es el apoyo del partido nacionalista vasco a los presupuestos

y las relaciones entre los partidos confundiéndola con lo que es la relación del gobierno vasco con el gobierno español en el ámbito de la representación institucional que nos corresponde

y por último sobre el autogobierno nuevamente el mercadeo con el partido popular y el deterioro del pacto se ha mostrado eso sí dispuesto a llegar a acuerdos

mil novecientos treinta y seis con un gobierno plural y por último otra vez

después a que nos comparemos tanto con europa como con españa y ha dicho usted que nos parecemos menos a europa y nos parecemos a españa y ha hablado usted de inversión en investigación en cultura en medio ambiente

la situación en cataluña en esta cámara hemos escuchado visiones diferentes sobre la realidad de cataluña desde la ruptura unilateral sin que se haya mencionado así hasta lo que

somos representantes políticos e institucionales y nuestra labor es ofrecer soluciones políticas e institucionales la situación

todo se está yendo de las manos es sumamente preocupante pero lo es más como decía en euskera

desde esta preocupación que creo comparte la mayoría de la ciudadanía apelo a restablecer con urgencia los cauces del diálogo la negociación y el acuerdo para lo cual en la medida de la situación general seguimos mostrando nuestra disposición defiendo que este conflicto político con alto arraigo social

el reto fundamental es evitar cualquier forma de fractura social o política cualquier riesgo y cualquier forma de fractura social o política ya se interna o entre diferente ámbitos territoriales o institucionales y siempre he defendido

un punto de encuentro cataluña estamos ante una crisis institucional

y horizonte incierto los puentes han sido dinamitados y es tiempo de reconstruir puentes es tiempo de política tiempo de buscar soluciones políticas a través de un proceso de diálogo que desemboque en una consulta legal y pactada

y el ejemplo del referéndum legal y pactado de escocia reino unido la complejidad del escenario actual

la responsabilidad también es de todas y todos la solución al bucle político en un ámbito tan sensible como la soberanía en el seno de la unión europea demanda la cooperación y la colaboración de todas y de todos demanda una auténtica voluntad de alcanzar acuerdos políticos y por ello además de

llevo trasladando desde el primer día y también desde la legislatura anterior a los ámbitos con los que he mantenido encuentros de trabajo ya sea el jefe del estado

ya sea el cuerpo diplomático mi objetivo es compartir una reflexión asentada en la responsabilidad institucional que permita abrir

nuevas respuestas a la necesidad de reconocer las realidades nacionales en europa y dar cauce de expresión a sus legítimas aspiraciones

contamos con ejemplos y modelos suficientes como para constatar que es posible conjugar el principio democrático y el principio de legalidad de manera

en un escenario de claridad de la capacidad de definir su propio futuro hau esanda beste aipamen bat izan da

tras diez meses de gobierno y recuerdo llevamos diez meses de gobierno damos cuenta del grado de cumplimiento de nuestro programa

y lo digo sinceramente sin autocomplacencias y con rigor este es un gobierno estable es un gobierno activo y es un gobierno exigente gobernamos en minoría sí

es necesario acordar es necesario también colaborar y agradezco el compromiso con esta forma de gobernar

de los grupos parlamentarios haciendo una visión negativa o catastrofista también en algún caso de lo qué es la realidad de euskadi yo creo que euskadi afronta su futuro

hasta antes de ayer y quiero recordarlo hasta marzo del año dos mil trece euskadi estaba en recesión en recesión

y la tendencia ha cambiado pero lo he dicho esta mañana no oculto los problemas porque no es suficiente a pesar de que la tendencia haya cambiado

pero estamos saliendo de la crisis por el esfuerzo de todos y afrontamos el futuro con una mayor ilusión y quiero reivindicar el esfuerzo que ha hecho este país en los momentos más duros de la crisis que no es precisamente la crisis más dura que ha vivido la comunidad autónoma del país vasco euskadi en estos últimos treinta y ocho años

uno los servicios esenciales los servicios esenciales sociales están garantizados están garantizados no hemos podido hacer todo

pero sí garantizar lo esencial el setenta y seis por ciento del gasto operativo del presupuesto corresponde a políticas sociales el setenta y seis por ciento

ciento setenta millónes más que el anterior destinamos a empleo y políticas sociales cuarenta y cinco millónes más que el año anterior

no ha habido recortes por mucho que quieran seguir extendiendo ese mantra

dos la economía crece y se crea empleo hemos estado cerca de las empresas con dificultades es cierto seguimos teniendo problemas

que arrastran problemas desde hace décadas desde hace décadas señor hernández señor martínez desde hace décadas no lo olvidemos hasta el primer trimestre de dos mil trece euskadi estaba en recesión hoy crece al tres por ciento y no lo olvidemos en marzo del año dos mil trece

y reconozco no es suficiente y tenemos que seguir y he dicho esta mañana no diré que hemos salido de la crisis hasta que podamos decir definitivamente que hemos recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la crisis

hoy tenemos una política industrial estamos impulsando nuevos sectores de actividad

hoy tenemos un ecosistema económico vasco más fuerte y más atractivo más competitivo tres en el ámbito de la convivencia tenemos un escenario de mejor convivencia desde el desarme de eta y señor alonso reconozco las carencias y he subrayado también los avances el desarme

unilateral efectiva y definitiva de eta que sigo exigiendo el consenso sobre el papel de las víctimas del terrorismo se ha reforzado

avanzamos en las políticas de memoria y me he pronunciado también contra el alejamiento de las personas presas cuatro

por primera vez todas las fuerzas compartimos un diálogo abierto multilateral en la ponencia de autogobierno y tenemos un guion y un calendario acordados y nos corresponde aquí en el parlamento

nos corresponde el primer paso presentar una propuesta institucional acordada y no tengo problema en hacer la aportación de mis reflexiones participadas esta mañana

tanto más ilusionante cuanta más capacidad de acuerdo demostremos aquí en el parlamento sobre el capítulo del presupuesto como también uno de los ámbitos abordados por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios

como un posible punto de encuentro y lo reitero pero primero una constatación el gobierno negoció el presupuesto del año dos mil diecisiete presente con todos los grupos y lo volveremos a hacer y el acuerdo no fue posible con todos no fue posible con todos pero quiero recordar que por ejemplo

como lo fue una posición radical de elkarrekin podemos en la primera conversación que tuvimos para la gobernabilidad de euskadi diciendo que el modelo económico social del partido nacionalista vasco en aquel entonces era radicalmente opuesto al de elkarrekin podemos y no era posible

y esto fue así señor lander martínez y quiero recordar en relación a lo que fue la negociación del presupuesto de este año dos mil diecisiete a eh bildu quiero recordar que eh bildu en el trámite

eh bildu votó a favor del setenta y cinco por ciento de las enmiendas presentadas por el partido popular al presupuesto

la situación es mejor más estabilidad más crecimiento más recursos se ha citado también la reforma fiscal

y llegar al máximo consenso posible mire señor alonso la posición del gobierno es clara y le leo literalmente lo que dice

un acuerdo que no traslade a las rentas medias y bajas una merma de sus ingresos y favorezca la competitividad de las empresas vascas esto es lo que dice nuestro programa se han citado recursos adicionales

actuamos con realismo en la medida de nuestras posibilidades mire pongo un ejemplo gráfico

en los parques tecnológicos y lo hace invertimos setenta millónes ofreciendo condiciones favorables a las empresas ahora bien señor hernández

particularmente el gobierno vasco ha recibido y ustedes hoy lo han podido ver también en los medios de comunicación el gobierno vasco ha recibido una advertencia de la unión europea recordando las limitaciones para las ayudas a empresas en situación de concurso de acreedores como es el caso de la naval y aquí hemos tenido experiencias de las vacaciones fiscales y hemos tenido experiencias del tax lease en el sector marítimo naval

industria en enkarterri se ha planteado también industria en enkarterri

la secretaria general del partido socialista de euskadi portavoz en la sesión de hoy ha mencionado en cuanto a lo que es también las zonas

la apuesta por la ampliación del parque tecnológico en la margen izquierda es un ejemplo y lo he citado esta mañana y vamos a seguir trabajando codo con codo con todas las instituciones públicas

no todo lo hacemos por los medios de comunicación o no todo se refleja en los medios de comunicación y esta misma semana señor martínez señor hernández esta misma semana se ha celebrado una reunión con alcaldes de la zona en la que también ha participado el gobierno también ha estado el gobierno vamos a valorar todas las opciones programa indartu mejoras de las infraestructuras y equipamientos

a través de financiación y avales actuaciones dirigidas a la capacitación y formación de las personas para responder a las necesidades industriales

hori da biderik egokiena negoziazio kolektiboa hobetzeko el empleo juvenil que también se ha mencionado el empleo juvenil es una prioridad nuestro compromiso es el ya reiterado

y todos los programas para ello están en marcha emprendimiento juvenil transición del mundo educativo al mundo laboral programas locales de empleo

formación dual tanto en formación profesional como en la universidad

y gracias a los planes de empleo ya se ha facilitado la primera experiencia laboral a cuatro mil jóvenes

en determinados departamentos pues bien hemos hecho un esfuerzo inmenso sin precedentes

nuevas plazas en salud educación y seguridad se ha mencionado cómo no

es una realidad es una realidad hoy las nuevas contrataciones son temporales ahora bien tres de cada cuatro contratos en euskadi

son fijos y el veinticinco por ciento temporales las inspecciones de trabajo del departamento de trabajo y justicia están revisando los contratos a tiempo parcial y el objetivo es detectar posibles fraudes y que las condiciones de trabajo mejoren hemos incrementado la plantilla de inspectores para mejorar esta labor

en el campo de los servicios esenciales sea protección social sea educación se han

lo que ya antes he contestado recortes en la renta de garantía de ingresos

no ha recortado en renta de garantía de ingresos al contrario y a pesar de que se ha hecho una mención sibilina al gobierno lópez y luego se ha querido escenificar o se ha querido identificar también lo que pueda ser responsabilidad de este gobierno ni en la legislatura anterior

al contrario cada año hemos destinado más recursos desde los cuatrocientos quince millónes de dos mil doce hasta poder superar los quinientos millónes de este año por primera vez tal y como lo ha reconocido el propio señor alonso y recuerdo que este es un derecho subjetivo

por lo tanto nada de hablar de recortes cuando estamos hablando de un derecho subjetivo que nos obliga a atender a todas las personas necesitadas en euskadi destinamos tres mil doscientos euros a cada persona beneficiaria de la renta de garantía de ingresos

la media en españa es mil quinientos euros la proporción de personas en hogares que no tiene recursos para gastos extraordinarios es del veintidós por ciento en euskadi

a esa europa a la que parece que no nos parecemos tanto ya si en euskadi es el veintidós por ciento la proporción de personas en hogares que no tienen recursos

treinta y ocho por ciento y en españa el cuarenta y dos por ciento la tasa de pobreza

y nuestro compromiso es situarla por debajo del diez por ciento en españa es del dieciocho por ciento

en la gestión de la renta de garantía de ingresos sí las he mencionado además esta mañana en la sesión de mi intervención primera hemos propuesto veinte acciones

y garantizar que las reciban aquellas personas que de verdad las necesitan pido prudencia y pido responsabilidad al hablar de fraude porque

y los cobros indebidos se deben en la mayoría de los casos señor alonso a cambios en las condiciones de los demandantes el control es permanente desde el año dos mil doce a este año pasado dos mil dieciséis

hoy el fraude se ha reducido al cero coma cuarenta y seis por ciento de la inversión y el uso inadecuado se ha reducido al cero coma treinta y seis por ciento

incentivar en todo caso incentivar la inserción laboral de aquellas personas beneficiarias además de lo que pueda ser la respuesta a las personas que de verdad más lo necesitan el objetivo tiene que ser también

y también en lo que es el objetivo de la renta de garantía de ingresos incentivar esa inserción laboral de aquellas personas beneficiarias con capacidad de hacerlo

en relación a la educación por lo tanto primero una constatación hemos incrementado cada año los recursos destinados a educación no ha habido recortes y las condiciones laborales son buenas

un reconocimiento tenemos que hacer autocrítica sí y esta mañana lo he planteado tenemos que hacer autocrítica hemos garantizado

un proceso abierto a la participación en torno a cinco cuestiones clave autonomía modernización convivencia lenguas evaluación el objetivo es estructurar y reforzar la estabilidad y calidad de la educación a través de su modernización

hemos reconocido y fui yo el primero junto con la consejera de educación ya en el mes de enero

y por ello hemos puesto en marcha la iniciativa global de formación para todos los centros con estos ámbitos prioritarios trabajo por competencias plan lector competencia en comunicación lingüística competencia científica y competencia matemática el gobierno va a fomentar la cultura de la evaluación sí de la evaluación con el objetivo de que contribuya a mejorar el sistema educativo

alderdi popularrari egindako gonbitean en relación a lo que pueda ser el apartado de la voluntad para defender

y en relación también con lo que he mencionado con respecto a cataluña esto no debe ser y no debe seguir así

y que se reconozca que españa vive la mayor crisis institucional desde la transición que el modelo de estado del café para todos ya no sirve que necesita una revisión en profundidad

la necesidad de abrir una reflexión serena y profunda sobre la realidad plurinacional del estado y su futuro señor alonso mientras se mantenga la unidad impuesta decretada en la constitución de cádiz

y de aquellos polvos estos lodos será difícil avanzar en una solución política creo que es urgente

y mediante el diálogo mantener así la situación es

e institucional y esto es lo que me parece realmente grave la fractura social y el cuestionamiento de la capacidad política e institucional

las aspiraciones mayoritarias de las sociedades española catalana y vasca eta honetan euskal bidearen aldekoa agertzen naiz

demokraziaren printzipioa eta legezkotasunarena uztartuz la vía vasca por lo tanto es cumplir el estatuto es actualizar el autogobierno es garantizar la bilateralidad es asumir la realidad plurinacional del estado

que conjugue el principio democrático y de legalidad creo que he abordado los ámbitos que

retos que euskadi afronta de cara al futuro vinculados también al presupuesto del próximo año dos mil dieciocho los problemas

la convivencia los derechos humanos el empleo el empleo juvenil la precariedad laboral el empleo público

de los grupos parlamentarios de los portavoces de los grupos parlamentarios que representan la oposición tanto el partido popular elkarrekin podemos

en relación a lo que es el modelo social me parece clave que nosotros desde el propio gobierno vasco digamos que

ni populismo intervencionista ni neoliberalismo ni populismo intervencionista señor alonso usted en la intervención nuevamente me ha retrotraído a discursos en los que yo identifico que se necesita negar la realidad para defender una posición

existencia de un problema territorial y de un problema político en el estado niega la realidad de un problema en cataluña la niega

a actualizar el autogobierno niega la realidad de una sociedad que está construyendo una convivencia con memoria crítica y comprometida con todas las víctimas también en el campo de la convivencia y los derechos humanos

más positivos en renta en sanidad en empleo en educación en innovación en protección social niega la realidad

y negar la realidad impide encontrar soluciones euskadi es la comunidad con mayor conocimiento de inglés de todo el estado señor alonso en relación a lo que ha dicho sobre el plurilingüismo sí señora lópez de ocariz

recurrir a hemeroteca para saber que euskadi es la comunidad con mayor conocimiento de inglés de todo el estado

y en cuanto al modelo social ya me he manifestado la recaudación

señor alonso sí la recaudación va bien pero cuidado cuidado con esta afirmación de que la recaudación va bien y por lo tanto

la recaudación va bien pero las explicaciones pueden ser en gran parte exógenas por ejemplo puede ser el pago a cuenta

derivado del acuerdo con el gobierno español habrá que analizar en el consejo vasco de finanzas próximo el once de octubre habrá que analizar lo qué es el iva de gestión propia

y hay que analizarlo con mucho detenimiento en relación a elkarrekin podemos

yo creo que no ha escuchado suficientemente la intervención de esta mañana creo que no lo ha escuchado suficientemente he citado la educación pública

he citado los programas de igualdad y en todo caso señor martínez ustedes participan en el consejo de dirección de emakunde el instituto vasco de la mujer y saben todo lo que se está haciendo en el instituto vasco de la mujer que es gobierno vasco

ustedes mismos participan de lo que es un consejo de dirección en el que pueden contrastar

he hablado también de las ayudas a las víctimas de violencia de género señor martínez he citado la prioridad de luchar contra la violencia contra las mujeres y también he citado el cuarto plan de igualdad por eso digo

he dicho que este es un compromiso compartido y he asumido que tenemos mucho trabajo por hacer lo he asumido esta mañana señora arana sí

no hagan ustedes demagogia porque quiero recordarles que euskadi ocupa el quinto lugar el quinto lugar de europa en el índice de igualdad de género

en el índice de igualdad de género en europa por otra parte señor hernández mire me alegra el nuevo interés de elkarrekin podemos como también luego lo ha subrayado el señor martínez por el sistema

he citado empresas en dificultades y he dicho esta mañana que las conozco

que las conozco y que reconozco además por los problemas por los que traviesan y me gustaría que esta nueva sensibilidad empresarial que ustedes manifiestan la extendieran

reconocimiento y respeto además del reconocimiento y respeto que merecen las treinta y seis empresas que puedan estar en situación de dificultad

decir en este pleno que cuando una empresa se acerca al gobierno vasco

nosotros como gobierno vasco analizamos primero si es local si viene con intención de invertir o si viene con un planteamiento de problemas en dificultades

se analiza la situación se analiza la situación

y si tiene interés en implantarse a corto plazo o a largo plazo

para la búsqueda de suelo para las herramientas y programas que podamos poner a su disposición entre ellos también el de la formación si resulta que las empresas que se acercan al gobierno vasco vienen con problemas o vienen a plantearnos problemas y vienen a plantarnos la necesidad de proyectos de inversión

lo que hacemos es si necesitan programas de ayuda y si necesitan programas de ayuda se hace un análisis y se plantea la colaboración y se preparan

y ya por fin si hablamos de las empresas que vienen a plantear problemas tenemos los programas que antes he mencionado bideratu

y analizamos la situación y analizamos la situación para definir las necesidades

a un seguimiento puntual son muchas más las reuniones que nosotros tenemos con directivos con empresarios con accionistas con comités de empresas

reunión que las dos partes entendemos que merece la pena ser

y cuando hacemos el seguimiento puntual hacemos el seguimiento puntual sobre la empresa sobre los contactos sobre los empleos sobre la situación sobre la refinanciación sobre si es un nuevo inversor o necesita un nuevo inversor sobre el circulante del que dispone sobre los avales sobre si está en situación de preconcurso

sobre si va a plantear un traslado y por lo tanto la necesidad de recolocación de los trabajadores si eso supone una reconversión si hay una venta de la actividad

para qué para analizar también los aplazamientos todo esto en orden a buscar soluciones y este es el trabajo en orden a lo que es una política industrial y en la relación con las empresas

del conmigo o contra mí tenemos la oportunidad por primera vez de trabajar juntos en la ponencia de autogobierno está bien que usted me emplace

le vuelvo a responder están muy bien las preguntas yo estoy dispuesto a hacer

a la ponencia de autogobierno y respetaré lo que diga la ponencia de autogobierno pero es en esa ponencia de autogobierno donde ustedes tienen que además de presentar su iniciativa que no sé si es la de habia la de

no sé si es la de la bilateralidad gradual no sé si es la de la bilateralidad por partes

en búsqueda de un estado confederal o una república confederal vasca es la que en cada uno de los ámbitos jurídico administrativo se tenga que seguir en este momento

la bilateralidad a reivindicar con el estado español para poder decir después que si el gobierno español dice que no no hay nada que hacer con el gobierno español y lo que realmente plantean es la confrontación

y en cualquier caso yo que esta mañana he abogado por lo que es la democracia representativa la democracia representativa y lo construido hasta ahora

desde el año mil novecientos treinta y seis por primera vez por primera vez y desde el año mil novecientos setenta y nueve insisto en que

tenemos la oportunidad por primera vez de trabajar juntos en la ponencia de autogobierno y nuestra responsabilidad compartida será

para articular un nuevo marco jurídico político la política significa mejorar en lo concreto beraz

gure proposamena errealista bideragarria eta irekia da en relación a lo que han sido también

de unos medios de comunicación o determinados titulares de medios de comunicación pues mire permítame el juego y que yo contraponga los titulares negativos a los que son los titulares que indican una visión en positivo nada de autocomplacencia pero tampoco

euskadi avanza y ustedes todas y ustedes lo saben porque estos meses han podido leer de la misma manera que yo aun cuando no lo quieran citar en este pleno

las empresas vascas baten record de exportaciones en el primer semestre la agencia fitch mejora la calificación internacional de euskadi euskadi es la comunidad que más invierte en educación la industria vasca en julio se sitúa en tasas interanuales de crecimiento de dos coma dos por ciento

la sanidad pública vasca a la cabeza del estado euskadi nuevo record de visitas turísticas el modelo vasco de protección social referencia en europa

y que tienen reflejo en los medios de comunicación esos que pasan más desapercibidos lógicamente para los grupos parlamentarios de la oposición son algunas de las noticias en positivo

pero tampoco catastrofismo y reitero euskadi avanza con realismo estabilidad y consenso mejora la situación económica y social vamos a mantener nuestra sensibilidad social porque siga habiendo

en las familias y en las empresas vamos a mantener la cercanía y el apoyo a la economía productiva real defiendo la estabilidad institucional y el acuerdo hemos firmado

comenzando por el propio gobierno vasco entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y se ha extendido una cultura de la colaboración y en este sentido señora mendia

permítame agradecer el apoyo del partido nacionalista vasco

tanto en lo que respecta a la ponencia de memoria y convivencia como también a la ponencia de autogobierno estamos gobernando con acuerdo estamos gobernando con un acuerdo con programa y con una responsabilidad compartida hemos puesto en marcha un gobierno en solo diez meses y estamos en disposición de cumplir los compromisos adquiridos ante la sociedad vasca beraz mendia anderea eta egibar jauna

bat egiteagatik eta bukatzeko esango dut que defendiendo la estabilidad institucional y el acuerdo sobre esta base debemos demostrar

educación reto demográfico y juventud innovación y digitalización internacionalización de euskadi es tiempo de un impulso político

que parta del reconocimiento también de la quiebra del modelo de estado vamos a facilitar el trabajo de la ponencia de autogobierno

en los cinco ámbitos de reflexión como reflexión que he citado esta mañana

debemos reconocer a euskadi como nación y considerar los derechos históricos como poder constituyente actualizar el autogobierno y avanzar hacia un nuevo estatus asentar la relación de igual

reclamo una nueva actitud del estado y reitero la salida del laberinto como decía esta mañana la salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del estado confederal

y podría hablar desde la constitución de cádiz a la que he hecho mención antes hasta lo que son los derechos históricos

reivindico la política otra forma de hacer política eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasatuz

gracias señora presidenta señor lehendakari la verdad es que confieso que me voy a ir otra vez del pleno

es el pleno importante que se hace al año donde se da cuenta de lo que se ha hecho

y luego también se nos propone qué va a pasar en el futuro y cuál es el proyecto para el día después

no sé a dónde quiere ir usted ni siquiera son coherentes

a nosotros nos ha dicho que está dispuesto a pactar después de enumerar todos los objetivos del bien común que podemos compartir que va a apoyar las industrias la felicidad la innovación en fin todo eso es imposible

pero después de hacer esas afirmaciones que están muy bien nos dice que le es indiferente llevarlas a delante con el partido popular con eh bildu o con podemos y verdaderamente es insólito y que por tanto va a iniciar un dialogo con todos y a ver qué pasa pero yo lo que

que no representamos proyectos políticos iguales ni parecidos sino exactamente el opuesto el contrario y que por lo tanto el gobierno con claridad tiene que inclinarse hacia una vía o hacia otra vía y si quiere nuestra colaboración lo lógico es que se aproxime las posiciones

no juegue con nosotros porque yo esto se lo digo en tono amable pero me lo tomo muy en serio

mire pues he pensado la reforma fiscal la vamos a pactar en las diputaciones con los de bildu que tienen más junteros y luego ya

tal hacemos pues eso no funciona así no funciona así y por tanto dónde vamos

un rumbo yo puedo compartir yo hago esfuerzo no soy nacionalista y es imposible no consigue ser nacionalista no sé a ustedes les resulta muy sencillo a mí no me sale no lo soy represento

pero yo estoy dispuesto a buscar lo que nos une y a compartir objetivos para hacer más fuerte a euskadi estoy dispuesto yo le pido que si va a hablar con nosotros o después de haber ensayado con

que se lance usted que no sea tan flojo que se tire

yo no le pido ninguna locura ni ninguna cosa rara pero sí que le pido

con claridad porque si no pues como hoy se llegan a los callejones sin salida claro en cataluña hay un callejón sin salida pero quién ha ido allí quién ha lanzado ese disparate ha liquidado su propio partido político toda su trayectoria democrática lo han liquidado van a perder el gobierno

de grupos que no se distinguen por su acerbo democrático desde mi punto de vista

fue terrible terrible a través de la imposición a la mayoría que impide

por ninguna tutela jurisdiccional que se pueda respetar es terrible gracias a dios yo espero y a la sensatez de todos que no tengamos que vivir cuestiones

de esas en este parlamento y que al menos lo que dice usted de la vía vasca esa que vamos pactar ordenadamente como dice usted

y de esa manera por la mañana nos ha dicho que vamos a ser una confederación por la tarde no ha insistido demasiado en ese asunto y luego me ha dicho a mí que estaba yo anclado en la constitución de cádiz y tiene razón que efectivamente fue la constitución de cádiz

en los españoles de ambos hemisferios ahí residía la soberanía nacional y

ya no residían el monarca no y entonces luego me lo mezcla con

porque allí hay una soberanía del parlamento el parlamento es titular de la soberanía el parlamento puede decidir en españa no entonces para que su propuesta de que hagamos una confederación de libre adhesión que

del señor egibar no lo ha llegado a decir vendría a ser como la ha comparado con la unión europeo una especie de unión hispánica de libre entrada

cada uno su brexit en el momento en que considere no esto es el proyecto pero para que ese proyecto fuera realidad yo no quiero reducirlo a lo absurdo habría que modificar la constitución proceso de reforma de la reforma dura de la constitución

se disuelven las cortes se convoca a un referéndum para perdón se vuelven a convocar elecciones nuevas cortes tienen que volver a aprobarlo y se convoca un referéndum para su aprobación la vía legal y pactada es muy fácil pero vamos a ver entonces que a mí todo me parece muy bien yo no he entendido muy bien el debate ni el rumbo al que vamos ni lo que va a pasar pero me quedo con su afirmación ahora lo vamos a llevar otra vez a la ponencia de autogobierno y les vamos a ayudar

yo no tengo prisa no tengo ninguna prisa si tiene que estar otros tres años

si lo tenemos ahora en una posición fantástica para dar un impulso nuevo a euskadi porque es verdad que tiene posibilidades de crecer yo porque le critico a usted o mis colegas de la oposición pues no soy ni catastrofista

hombre no lo soy pero mi obligación es señalarle también las cosas que no funcionan bien y para las que usted no está dando respuesta lo he intentado

en aquellas materias que me parecía más fundamental algunas cuestiones sociales decisivas la rgi donde no reconocen porque tienen

la realidad o en materia de educación donde usted ahora reivindica las evaluaciones y eso a mí me gusta porque eso es lo que nosotros propugnábamos en materia educativa cuando impulsamos la ley

naturalmente evaluaciones y cualificar bien a los docentes porque eso es lo que mejorará la educación ya podemos trabajar juntos en apoyo también de la realidad educativa del país

de los jóvenes estudian en la red concertada tenemos una distribución cincuenta por ciento la distribución de recursos es setenta por ciento la red pública treinta por ciento la concertada por lo tanto

la red pública que recibe la mayor parte de financiación y yo le pido también que fortalezca y que cuide esa realidad del país

no ha convocado plazas en inglés pero ya entiendo que desde su punto de vista el inglés se aprende en casa pero es que mucha gente que no puede aprender el inglés en casa porque no tiene dinero

yo quiero colaborar con ustedes de verdad

y me gustaría poder llegar a acuerdos pero claro para eso cuando tengan a bien y si saca usted un rato

verlo un día y ver exactamente qué piensa en porque a lo mejor en la intimidad podemos hablar en euskera

el señor egibar se ha empeñado en decir que los catalanes le quieren más al pnv que a los de bildu

y que además él en el fondo es mucho más nacionalista que ustedes porque eso es lo que entonces ahí hay una competición en la que yo no puedo participar de ninguna manera claro cómo me mirarán a mí

y en fin cuando se plantea la posición de los grupos para la reforma del autogobierno

es erigirse él como poder constituyente en toda españa y hacer su constitución

el partido socialista quiere hacer un estatuto de autonomía clásico

pero una cosa clásica al uso por la vía normal no y está bien

que no merece la pena meterse en ese vericueto cuando las cosas según dice usted van muy bien y si van muy bien para qué lo vamos a estropear pero mire lo que está pasando en cataluña tomemos nota vamos a mantenernos en la sensatez vamos a darle muchas vueltas a ese asunto y quizás en nuestra generación veamos como eso se resuelve o quizás

me dice que no entiendo la realidad y cuando le digo que una cosa va bien que es la recaudación me lo niega me dice que no va tan bien que es la única cosa que le he dicho que va bien

no va bien hombre yo creo que es razonable que hagamos alguna medida para apoyar a la sociedad que es la que crea empleo que es la que crea las empresas que es la que crea la riqueza

consejero de sanidad que si no hay mata no hay patata que si no hay crecimiento actividad económica y riqueza no hay dinero para pagar

espero que me aclare alguna vez su rumbo y sobre todo espero que no lo cambie sustancialmente respecto de lo que hemos podido hacer el año pasado

y que las cosas pueden ir a mejor yo esa es la oferta que le hago apoyémonos en lo que va bien

igual de buenas y no nos metamos en líos que no necesitamos muchas gracias señora presidenta

bueno está bien señor alonso tener un poquito del club de la comedia también para distender

bueno en cualquier caso los socialistas hemos querido que este pleno fuera de certezas y compromisos y que estén sobre la mesa todos los asuntos que van a requerir el esfuerzo de todos

y eso supone admitir al otro al que piensa diferente y no exigir a nadie que se cumpla íntegramente los programas de cada cual

porque no debe ser así porque también los ciudadanos hace un año no concedieron a nadie la capacidad de tomar decisiones en euskadi sin contar con los demás a nadie

ni sociales ni por supuesto tampoco de carácter identitario ni de sentimientos de pertenencia

que se compromete además ha respetar el ordenamiento jurídico vigente incluso para cambiarlo pero eso sí sin saltárselo unilateralmente como por desgracia se ha hecho en cataluña y aquí ha habido un intento es verdad de convertir este debate en una especie de monográfico sobre cataluña cosa que ya preveíamos

y es verdad que es muy grave lo que ocurre allí es verdad que la dejación del gobierno de españa la inacción

muy podrida pero es gravísimo también que las instituciones catalanas se salten sus propias leyes que sea el propio parlamento catalán el que haga saltar el estatuto catalán por los aires

y que se pretenda aniquilar lo básico de la democracia que es el diálogo el acuerdo y el respeto a las normas y gravísimo que se quiera anular el debate sobre lo que necesita euskadi para defender

sino a los independentistas catalanes es decir a una parte de la sociedad catalana eso se ha pretendido también hoy aquí pues a nosotros nos parece que viendo lo que está pasando en cataluña nos ratificamos en que la apuesta que hemos hecho en euskadi por el acuerdo entre diferentes

que podemos hacer en nuestra convivencia yo sé que algunos como los señores de bildu son más partidarios de buscar los acuerdos entre iguales cosa que es bastante fácil para después

ese no es nuestro modelo ni lo va a ser nunca y aquí se ha hablado también del derecho a decidir no voy a descubrir nada cuando les digo que los socialistas no somos partidarios

y que en realidad lo que se quiere decir es el derecho a la secesión porque nos parece que no está reconocido aunque ustedes se empeñen en decirlos en algunos ocasiones por el derecho internacional de ninguna manera

en este país de decidir qué queremos hacer con la rgi

adaptada a una nueva realidad demográfica de envejecimiento tenemos el derecho a decidir sobre la educación que garantice a todos y cada uno de nuestros jóvenes que de verdad tendrán una oportunidad real para vivir dignamente en un mundo que les va a tocar protagonizar a ellos cómo reorientamos la cualificación de nuestros trabajadores para que se adapten a la realidad tecnológica en marcha con garantía de derechos laborales

conseguimos que nuestra radio televisión pública sea sentida como algo de todos eso es un deber de decidir esas cosas

para que de verdad sea útil a los ciudadanos cómo construimos una sociedad sobre el suelo irrenunciable para nosotros y espero que para la mayoría de que aquí cabemos todos

por pensar diferente tenemos muchos deberes mucha responsabilidad por delante y muchas decisiones que tomar para garantizar que muchos derechos que afectan a todos como paralizarnos solamente por el derecho a decidir que plantea una parte de los ciudadanos bueno por hacer mención a alguna de las cosas que se han dicho aquí yo le quiero reconocer al pp

las tablas y han sido hábiles a la hora de situarse políticamente en esta cámara es verdad yo tengo que reconocer que con sus aportaciones

y además han sido votadas y pactadas en muchos casos con estos dos señores al que el pp demoniza en muchas ocasiones con podemos y con bildu han tenido el apoyo y probablemente gracias a ellos por ejemplo se han podido consolidar las compensaciones por el repago farmacéutico las ayudas a la pobreza energética el derecho a la vivienda en fin estas cositas que intentan entre otras cosas sanar las heridas que ha ido provocando el gobierno de rajoy

parecen querer ser oposición constructiva y nos parece bien son oposición pero no son la única oposición de este parlamento nosotros somos gobierno

y además marcamos a partir del pacto con el pnv cuál es la guía para definir nuestra política fiscal lo ha explicado el lehendakari esta mañana y nuestro modelo de protección social y también marcamos cómo debe cumplirse la ley y cómo debe cumplirse el estatuto por eso le sugiero

se lean el texto porque creo que deberían alegrarse de que el gobierno

quiera atenerse a lo que ya se comprometió hace cuarenta años

porque lo que se pide en ese informe que ha hecho el gobierno sobre las transferencias es copia literal de lo que dice el estatuto de gernika no hay ningún invento raro ni nada que no este escrito

al estatuto a podemos simplemente alguna pequeña referencia hacía referencia el señor martínez a que el partido socialista no quiso votar la moción de censura que presentó el señor iglesias yo solamente le quiero decir que a esa moción de censura teníamos que no haber llegado

y no hubieran votado en contra igual que los señores de bildu por cierto que también lo hicieron si aquello se hubiera producido y ustedes no quisieron hacerlo no hubiera habido lugar a ninguna moción de censura porque el señor rajoy ya no hubiera sido presidente pero cada cual tiene su pecado original

porque no se me va a olvidar después usted hace referencia a las aportaciones que ustedes hacen a la ponencia de autogobierno y que yo reconozco desde el punto de vista de querer darle una dimensión social al autogobierno algo que es copia literal de lo que dice la propuesta del partido socialista presentada como la del pnv hace veinte meses en este parlamento léanselo ustedes creo que ya la han leído porque algunas de las expresiones son copia literal

y bienvenido sea la noticia de que coincidimos en este tema pero quiero pensar que eso no sea solo un ropaje para que ustedes acaben comprando el discurso

estén presentes bien respecto a lo que trasladaba bildu

la firme intención de bildu de hacer marcaje no tanto al gobierno sino al partido nacionalista vasco es como una especie de tensión entre los dos partidos nacionalistas de esta cámara

y de los catalanes pues es una especie de competición de a ver quién hay más nacionalista que otro pero

podremos contar entiendo con la izquierda abertzale para acordar políticas en materias

las propuestas que se hacen desde el gobierno en materia económica y social por supuesto y vamos a quedarnos con que no van a tener nuevas dudas sobre si se implican o no

y aportar en beneficio de todos porque no queremos pensar que si esta tentación que ya apuntan de acudir cada jueves y cado dos viernes al comodín catalán

vaya a ser la que pretendan que marque este curso que ahora arrancamos ustedes ya les han mostrado su solidaridad plena a los independistas catalanes y nos habría gustado también que se la hubiesen mostrado

en este momento o por ejemplo a los alcaldes señalados con el dedo por algunos por no seguir las instrucciones del gobierno independentista catalán y pensar de otra forma

su solidaridad con los socialistas vascos cuando nos pintan las casas del pueblo y hasta las txosnas en recintos festivos con dianas y con goras a eta o cuando llamar español a alguien se sigue considerando en este país un insulto sí

de otros vascos parece que no ha llegado aún el día de su solidaridad pero créame que seguimos esperando que eso llegue y estamos esperando y además estamos convencidos de que así será

hacer un monográfico sobre euskadi pero es verdad que compartimos la preocupación de lo que les ocurre a los catalanes y eso nos sirve para ratificarnos en el camino que iniciamos hace un año

por el acuerdo para solucionar problemas cotidianos y afrontar los retos del futuro

la inmigración o la globalización no valen respuestas sencillas ni respuestas univocas esas ya las tiene trump

en cataluña nosotros pensamos que hace falta más trabajo más reflexión y sobre todo más acuerdos empezamos este curso con una base sólida tenemos en nuestra agenda la agenda del conjunto de la ciudadanía vasca la nacionalista y la no nacionalista también

el pnv compartió esa decisión y de forma conjunta hemos aportado a la ciudadanía una estabilidad que permite afrontar las reformas que nos permiten resolver las cosas de hoy y sentar las bases de para el futuro

volviendo a mostrar nuestra mano tendida a todos los grupos políticos de esta cámara sin excepción para llegar a acuerdos en todas las materias sin vetos ni exclusiones

nunca va a ser la de democratizar el estado o la de reformarlo en clave de plurinacionalidad porque ustedes perderían su papel sus diputados no tendrían esa llave en madrid que tanto

del bipartidismo ustedes necesitan al partido socialista y al partido popular ustedes curiosamente no son nada sin esos partidos centralistas que tanto critican se vio en la investidura de sánchez y se vio en la moción de censura de rajoy

a ciudadanos a coalición canaria a foro asturias y a upn para aprobar el techo de gasto del estado en dos mil dieciocho lo mejor de cada casa hablando de futuribles como ha dicho usted antes pero

que yo pensaba que la réplica a la oposición la hacía el lehendakari pero aceptamos que tus cuatro minutos se descuenten del tiempo del lehendakari que

limitado también juraría que el lehendakari esta mañana nos ha venido con la cuestión de europa con la cuestión del modelo europeo y lo digo

que el pnv iba a comparar nuestro sistema de protección social con europa y no con el resto del estado yo le sugiero que comparemos lo que invertimos en salud o educación en relación al pib en euskadi y lo que invierte la media de europa

o comparar las medidas que toman unos junto con europa sino con las medidas que toman otros

bien parados ya sé que esto escuece pero es que esto es una realidad ustedes no fueron

no lo fueron no lo fueron por más que quieran arrogárselo no falten a la verdad fue la ciudadanía fue la ciudadanía quien promovió una iniciativa legislativa popular pidiendo la renta básica y fue esa iniciativa

la base de este sistema de garantía de ingresos que se ha desarrollado durante treinta años y que efectivamente ahora se está viendo recortado porque se ha quitado la equiparación con el ipc

a pesar de que se recortó con la excusa de la crisis pero entremos a más cuestiones se ha referido

nosotros lo que hemos planteado es que usted de hora y media de discurso le ha dedicado

a esta cuestión y efectivamente estamos en el consejo de emakunde y sabemos lo que se hace y sabemos lo que no se hace pero sabe cuál es el porcentaje del presupuesto del gobierno vasco que se dedica emakunde el cero coma cinco por ciento

quinientos ese es el porcentaje que se le dedica a emakunde el cero coma

y luego sigamos por la política industrial ustedes hablan de incrementar el peso de la industria en un veinticinco por ciento del pib cuando antes de la crisis

qué tipo de planes industriales presentan que no contemplan recuperar lo perdido por lo perdido por la crisis y encima

que hablan con qué agentes económicos hablan para plantear este tipo de planes industriales cuando todos los sindicatos sin excepción ela lab comisiones obreras ugt y esk critican su política industrial algo estarán haciendo mal

cuatro punto cero no es solo eso tan importante como la renovación tecnológica que lo es es la renovación de las relaciones laborales en la empresa es preciso un cambio en las estructuras de gestión para incorporar todo el talento y el conocimiento la empresa del futuro

del empresariado vasco pónganse a ello de verdad invierta algo en contenido y menos en marketing y respecto a la naval que otra vez

no vemos medidas concretas pero no se preocupe porque nosotros sí tenemos medidas sí tenemos alternativas y sí planteamos soluciones que de hacer declaraciones vacías como ha hecho el gobierno y en las antípodas del abandono del partido socialista de la margen izquierda y de la naval

y que sirven para la naval pero que también pueden servir para otros casos

son cuarenta cincuenta pymes de la margen izquierda que dan empleo a quinientos personas

asesoramiento y acompañamiento para reducir su dependencia de la naval la segunda que es impedir a través del propio ayuntamiento de sestao cualquier

apostar por el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo de calidad

una acción concertada entre el gobierno vasco y el gobierno central en el capital social de la naval asegurando el control público de la inversión hacer un plan

asegurar el pago de salarios del personal contratado doscientos quince personas y subcontratado que son otras mil ochocientos cuarenta entregar los buques comprometidos

y sabe por qué no hay un problema en invertir dinero público en la naval porque yo sé que a usted se ha referido antes a aquellos problemas de devoluciones de dinero que ha podido haber o la advertencia que ha venido por parte del europa

existe la posibilidad de dar ayudas para favorecer el desarrollo económico de regiones que el nivel de vida sea anormalmente bajo

de la margen izquierda pero además hay otra cuestión más que es que en europa ellos no miran ellos lo que miden es si se están dando ayudas públicas o

entra en la empresa en las mismas condiciones de riesgo que el de capital privado

y esto lo ha dicho el mismo almunia en dos mil once cuando se planteó hacer esto con la naval no quiero dejar tampoco pasar señor lehendakari la cuestión de la fiscalidad que antes no hemos comentado y ahora sí que nos tocaría ha hablado usted señor urkullu de la necesidad de un acuerdo entre los partidos para la reforma fiscal sin embargo quizás deberían de empezar ustedes haciendo entrar en razón al señor rementeria

por todas que como decía el señor azpiazu hay margen para recaudar más y hay necesidad de recaudar más entonces me gustaría saber con qué modelo se queda usted si con el planteamiento de rementeria o con el de urkullu

o si no lo hay y es que esto no solo ocurre en el ámbito de la industria y el empleo es que es extensible a otras políticas del gobierno y ahora ya vamos al autogobierno

que es que yo estoy convencido de que el partido socialista no firma todo lo que ha dicho hoy el lehendakari

pero bueno como todos nos podremos poner de acuerdo también le anticipo un titular

hay cosas en las que nuestras propuestas de estatus son cercanas nosotros también vamos a hablar

hablar de libre adhesión y vamos a proponer también como referencia el modelo canadiense que tanto hemos defendido y que tanto ha defendido esta coalición desde las pasadas elecciones

muy lejos para nosotros ese estatus no es lo más importante la clave es hacer del autogobierno una herramienta al servicio de lo social

pasa por cambiar la arquitectura institucional de euskadi en particular la ley de territorios históricos nuestra propuesta pasa por tener instituciones más transparentes cercanas y participativas pasa para avanzar en el derecho a decidir y poner instrumentos efectivos

con el partido socialista en relación con el autogobierno le digo señor pastor lo que respondía a su compañero

de qué careces han sido un ejemplo de todo menos de respeto a la plurinacionalidad del estado

al buen trato del actual estado autonómico o de cómo abordar las demandas de una buena parte de la sociedad catalana sus palabras pierden credibilidad ojalá defendieran la dimensión social y el autogobierno ojalá defendieran el estatuto

ustedes hoy aquí pero es que hoy nos hemos encontrado con que sus compañeros del partido socialista de aragón

están maniobrando para impedirnos hacer un encuentro en zaragoza entre cargos públicos para hacer la situación de cataluña ese es su ejemplo de diálogo su forma de diálogo y efectivamente no votamos la primera vez a pedro sánchez porque no queríamos un gobierno

por ciudadanos el partido más centralista que existe

este estrechaba con la otra mano el cuello de las instituciones catalanas

no compartimos las vías unilaterales no son nuestra opción pero eso no puede ser obstáculo para situarse en contra de cualquier limitación de derechos fundamentales como son el de reunión

no es un buen camino para avanzar pero debe quedar claro que el problema no es la ciudadanía del resto del estado y el problema no son el resto de pueblos comunidades y naciones del estado el problema son el partido popular y el silencio cómplice del psoe

nuestros grupos son los más opuestos en el modelo socioeconómico hace unos meses se publicaba que el partido nacionalista y elkarrekin podemos somos

en el parlamento en cuanto a lo socioeconómico y que fundamentalmente lo hacemos cerca

señor lander los diputados los diputados del pnv en madrid somos decisivos

no haya presencia del partido nacionalista vasco en el congreso y en el senado

sino porque habrá un parlamento de la nación vasca y estaremos en las elecciones europeas llegará el día veremos a ver qué es lo que pasa con otras formaciones políticas

porque es insistencialista usted también contumaz no venga a persistir en el error venga a plantear de nuevo

entonces aquel fue un acto compartido pero de cobardía política en política hay que enfrentarse a los temas y ustedes

los contenidos no los presupuestos generales del estado traer el acuerdo

si algunos de los extremos y contenidos de ese acuerdo vais a votar a favor

o vais a votar en contra de las liquidaciones y de actualización del concierto decirlo

eso fue un acto de cobardía política bien admíteme el término

en el tema del autogobierno está claro porque tienes un amigo

diciendo que idoia mendia no asumiría lo de iñigo pero que iñigo tal tal tal solución quiero hablar con tu amigo

quiero hablar con tu amigo y a ver si no aclaramos señor

y me viene bien con el estatuto catalán porque usted dice yo no soy nacionalista yo creo que un nacionalista

se autodefine como nacionalista furibundo español comprende al nacionalista vasco comprende al nacionalista porque es un buen nacionalista español el problema de quienes dicen que no son nacionalistas es que en el fondo y usted fíjese ha hablado de los dos hemisferios de la constitución de cádiz es que en el fondo son imperialistas

ese es el problema porque todo el mundo tiene una nación

y si defiendes una nación tiene que defender también la nación

late el toque imperialista por qué en cataluña también

previo antes de la republica que ya decían los nuestros y algunos catalanes también que no hay cosa más parecida a un español de derechas que a un español de izquierdas no pues cuando

la republica había un borrador de estatuto

con una serie de contenidos y también tuvo su correspondiente cepillado

adecuar pero hay un debate interesante entre manuel azaña

y manuel azaña dice que se ha fracasado en el intento de asimilación de cataluña

un mensaje de otra longitud de onda y viene a decir que el problema catalán no se puede resolver no se puede resolver porque desde antes de que existiese la unidad peninsular y persistirá mientras españa subsista y sin pretender sin pretender que españa se suicide yo lo que sí creo es que puede haber o pueden coexistir convivir distintas naciones y eso es lo que dice ortega y gasset ahí se acaba la cita sí lo que dice

perpetuo que hay que conllevar la palabra clave es conllevar de ahí la teoría de la conllevancia o sea o resolver los problemas a ver si se pudren yo creo que cataluña está poniendo en este momento

asusta la contabilidad democrática al parecer al partido popular pues lo que los

debe tener un valor desde una posición democrática un valor relevante para un estado que no ha hecho ni una oferta ni una oferta política

para estimular o probar una oferta política ninguna durante siete años con aquella teoría de que bueno los problemas existen pero se pudren y ya vendrá otro tiempo pues no

y el conflicto político institucional ya tiene un desbordamiento democrático

es que no no voy a decir que sean dignos o no de estar en la política pero por lo menos

mínimamente qué es lo que está sucediendo en cataluña que hay un desbordamiento democrático

hay que dialogar hay que hablar que la convivencia no se puede imponer hay que pactar entonces si uno se cierra a todo cierra la puerta del diálogo cierra pues cataluña va a contribuir efectivamente a que se democratice el estado

un boquete impresionante en ese muro de intransigencia y de autoritarismo del partido popular lo van a abrir lo vamos a ver

las cosas van a ser muy diferentes muy diferentes y desde luego positivas para cataluña y para nosotros también

se pueden alcanzar acuerdos y tener esquemas de convivencia política eta azkenekoa